consejero señorías egun on el grupo socialista va a respaldar el acuerdo alcanzado entre la proponente y el grupo nacionalista

porque nos parece y no nos podemos oponer a este acuerdo de mínimos

es un acuerdo de mínimos poco ambicioso y reconozco que me ha sorprendido por parte de eh bildu porque no nos importa reconocer que este grupo ha sido insistente con la cuestión del deporte

y de hecho nosotros hemos querido recuperar ese espíritu en la enmienda que no ha sido recogida avalando

hace unos meses en la comisión de control y el espíritu que parecía inspirar el segundo plan de igualdad de la radio televisión pública vasca

un espíritu que no está presente en el contrato programa firmado hace dos meses aunque mi compañero

se referirá luego en esta cuestión en los compromisos que adquiere e i te be

y en el cinco punto seis punto cuatro el de ofrecer una ventana al deporte femenino que luego nos concretará a pesar de que cuando se firmó este contrato programa cuestiones como

ya estaban sobre la mesa por eso nos ha sorprendido

quizás junto con el retraso de elevar esta cuestión a pleno a pesar de que en noviembre eh bildu planteaba su urgencia tiene más que ver con la oportunidad u oportunismos de que ayer mismo comenzara esta prueba

de uno y no de otro creo que a los organizadores les hubiera gustado algo más

no es solo cuestión de leyes es verdad que han sido necesarias diversas leyes para que socialmente se aceptase el derecho de la mujer a ejercer una igualdad en cualquier actividad incluida

y en la de los medios de comunicación nuestra petición es llamar igualdad igualdad real ya que la realidad dista en muchas ocasiones y en muchos aspectos y para conseguir los objetivos además de mostrar deseos

de la mujer en nuestra radio televisión hoy las noticias deportivas exclusivamente femeninas publicadas por ejemplo en la prensa escrita vasca no llegan al cinco por ciento del total según un estudio del gobierno vasco que concluye que el tratamiento del deporte practicado por mujeres en la prensa escaso pobre e inadecuado por lo tanto nos preocupa y nos importa

una carrera ciclista femenina profesional de primer nivel

es una competición por etapas y que todos los recorridos se realizan en euskadi la organización trabaja para garantizar una buena participación

las participantes que se presentan en la prueba ciclista cuentan con un renombre

y es lo que nos da proyección fuera es lo importante también y lo que al margen de nuestra apuesta por la igualdad debe interesarnos también

por eso es necesario que etb vaya de la mano de esta carrera por etapas para asegurar su continuidad y si este año etb ofrecerá los resúmenes y retransmisiones exigidos por la uci y que es una continuidad

que se garantice y se garantiza para el año dos mil diecisiete pero nos preocupa lo que ha costado lograrlo nos preocupa que todavía

con tantos obstáculos para que las mujeres tengan una vivencia igualitaria en el deporte y en los medios de comunicación ha faltado sensibilidad

la que ha acudido al gobierno vasco en busca de la ayuda necesaria para que se pueda realizar la veintinueve edición y la aportación ofrecida

una cuantía a nuestro modo de valorar y de la organización muy escasa para cubrir las necesidades que precisan los organizadores de la carrera ciclista femenina

en el dos mil quince contó con la ayuda que la dirección de deporte destinó a la vuelta del país vasco masculina

euros según fuentes del gobierno en referencia

en la competición que mujeres ciclistas podría tener un coste de cincuenta mil euros entendemos que es necesario realizar

en esta vuelta al país vasco la igualdad real se debe ver en apoyos reales el gobierno vasco debe establecer normas

y podamos encontrar una igualdad efectiva en e i te be como medio público de comunicación que debe actuar con una gran responsabilidad

y carencias las mujeres los poderes públicos vascos

en todas sus políticas y acciones de modo que establezcan en todas ellas el objetivo general de eliminar la desigualdad

un mayor compromiso con gran eficacia eficiente y equitativo e i te be debe garantizar la difusión de las actividades deportivas políticas sociales y culturales promovida o dirigida a mujeres en condición de igualdad queremos hacer hincapié

en torno al espacio y tratamiento que los medios de comunicación dan al deporte femenino se deben dar mayores pasos y trabajar por una igualdad efectiva el grupo socialista una vez más

defiende el derecho de la mujer y los colectivos desfavorecidos en el tratamiento deportivo integrador si hablamos del segundo plan de igualdad en e i te be hablamos de un plan específico con objetivos y medidas concretas

es el cumplimiento por parte del gobierno de la ley efectiva de la igualdad en este caso en el deporte que actúe el gobierno con responsabilidad

esa es nuestra petición el grupo socialista se pregunta cómo se va a conseguir eliminar todas las barreras y estereotipos entre los denominados deporte masculino y femenino el trato no es el mismo señorías hablamos de ciclismo de remo

de balonmano de judo de boxeo entre otros

en los planes de acción positiva para las mujeres se ha ido a remolque

el gobierno debe liderar no ir a rebufo de quienes le reclaman insistentemente que contribuya a esta igualdad nada más y muchas gracias

buenos días gracias presidenta lehendakari miembros del gobierno

brevísimamente porque estamos de acuerdo con la enmienda de transacción nosotros no habíamos presentado enmienda de totalidad al texto inicial estábamos de acuerdo

está bien claro que no podía ser de otra manera para qué tenemos la televisión pública

para que la carrera ciclista femenina más importante que hay en españa pues se difunda

que en este país son muchos el deporte

sostiene la etb no es que

haga un favor a la emakumeen bira sino que es al revés el hecho de que haya acontecimientos deportivos tan importantes en euskadi como es

etb tenga una buena noticia en ellos por eso mismo yo creo que tenía que haber más

debatir en el parlamento cuestiones como esta sino que tendría que ser de oficio la propia dirección de e i te be quién asumiese este asunto como una buena noticia para el propio

vuelvo a decir nosotros no habíamos hecho enmienda de totalidad por compartir el texto inicial

se comprometa más aún de lo que lo hace con el deporte con el deporte femenino compartimos absolutamente los planteamientos que ha hecho la representante del grupo socialista en relación con el papel que e i te be tiene que asumir de reflejo y del deporte

yo creo que ha sido una buena idea lo cierto es que nos chocaba que una proposición no de ley presentada el veintisiete de noviembre

a la vista de la edición de la emakumeen bira se haya retrasado hasta hoy hubiese sido mejor

hubiese sido un escenario mejor para pero bueno

en cualquier caso nos congratulamos del acuerdo vamos a votar a favor
de la enmienda de transacción muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

litezkeela de repente a finales del dos mil quince nos encontramos en los medios de comunicación con la triste noticia que la uci deja fuera de la world tour

por lo visto la causa que se achaca es que no se retransmiten las etapas por televisión a pesar de no estar claro esto último porque no se retransmiten muchas carreras dentro del calendario citado a las ya numerosas preocupaciones existentes para los organizadores ahora se sumaba una más

sailburuak hemen bertan honela esan zuen estamos en contacto tanto con los organizadores de la prueba como con e i te be para analizar las posibilidades existentes al respecto y haremos lo posible por que esta prueba esté el próximo año en el calendario world tour femenino geroztik

emitituko ahal izateko nuestro grupo en noviembre cuando se registró la iniciativa presentamos una enmienda a la totalidad donde instábamos al gobierno

lleven a cabo las gestiones pertinentes con la uci y acuerden la solución idónea

a la señora fresno le diría que para ser un acuerdo de mínimos como ha dicho aquí

casi todo lo que se pedía en la iniciativa inicial

para que eso se consiga para los años posteriores besterik ez eskerrik asko

brevemente para decir que estamos de acuerdo con la iniciativa con la transaccional y que votaré a favor de ella gracias eskerrik asko maneiro jauna

el debate que estamos tratando es sobre la ayuda que debe dar el gobierno y e i te be en la emakumeen bira y efectivamente

y vamos a respaldar el acuerdo alcanzado pero desde luego tenemos derecho a decir que para nosotros es un acuerdo de mínimos un acuerdo necesario pero poco ambicioso debemos recordar que han sido necesarias diversas leyes

a ejercer en igualdad cualquier actividad incluida la deportiva pero la realidad dista mucho de ser igualitaria en este aspecto porque todavía hoy en día nos encontramos con grandes obstáculos

eso nos debería hacer reflexionar hemos heredado una serie de perjuicios y creencias

razonamiento empírico que dificulta el que las distintas leyes impuestas a favor de la igualdad se acaben reflejando de forma clara

porque nuestra comunidad autónoma cuenta con un amplio recorrido en el desarrollo de políticas públicas de igualdad desde la creación de emakunde en mil novecientos ochenta y ocho tenemos aprobado

y todas ellas integradas en la cultura y el deporte

hay carencias el plan real sin las carencias que están sufriendo nuestros equipos de competición y los organizadores de las pruebas hoy nos toca

el gobierno debe tomar buena nota de que los equipos femeninos en el deporte y en especial

deben tener mayor ayuda económica y apoyos en los medios de comunicación y menos desigualdades debe existir menor grado de desigualdad entre los equipos masculino y femenino si no como sociedad avanzaremos muy poco si no

de las mujeres en el deporte de competición de qué manera uno de los objetivos por parte de e i te be de forma progresiva

dando un tratamiento informativo adecuado y digno y no estereotipado tanto en informativos programas deportivos y retransmisiones deportivas contando con todos los medios materiales y humanos necesarios y en especial en eventos

la cobertura televisiva es exigencia indispensable para ser reconocida internacionalmente desde el grupo socialista

que se da al deporte femenino se deben dar mayores pasos y trabajar por una mayor igualdad efectiva dando la cobertura que se merece

eso estoy de acuerdo en lo único que estoy de acuerdo el once de mayo cuando aquí se presentó el director de deportes y juventud que presentó el estudio

el señor redondo hacía referencia a los medios escritos no hizo ninguna referencia a e i te be para empezar

unos datos le voy a dar tanto que hablaba de la retransmisión en televisión

mire en el dos mil once con alberto surio se dieron trescientos setenta y nueve noticias

ochocientos cincuenta y tres y en el dos mil catorce también con maite iturbe setecientos ochenta y tres

por lo tanto un poco de rigor yo lo que creo es que usted en esta iniciativa se ha equivocado

y ha querido meter el tema de la igualdad de los planes de igualdad y entonces no ha acertado por lo tanto nada más eskerrik asko

buenos días la ley de vivienda ha

inicio desde el primer día ha estado acompañada de polémica por diferentes motivos pero si ha habido uno que ha caracterizado el que ha seguido esta ley hasta su aprobación definitiva ha sido el hecho

de ser una ley que se aprobó sin el concurso del gobierno es decir sin lo que habitualmente son las mayorías que apoyan a un gobierno es decir fue otra mayoría

este hecho paradójico daba lugar a la impresión nada aventurada de con qué voluntad y con qué espíritu desarrollaría reglamentariamente el gobierno dicha ley esa preocupación estaba basada lógicamente en la reiterada oposición que el gobierno hizo a los contenidos más emblemáticos de dicha ley esos temores pudieron desterrarse si quiera momentáneamente cuando el dos de octubre

acerca de cómo pensaba defender las competencias del gobierno

frente a los eventuales recursos de inconstitucionalidad que el gobierno de españa planteaba y de resultas de aquella contestación pues efectivamente

entendía que la norma emanada de este parlamento atendía

la función social de la vivienda era una de ellas este momentáneo instante por el cual esas preocupaciones pudieron desvanecerse

enseguida volvieron de nuevo a asomar a nuestras impresiones cuando llega el momento de desarrollar reglamentariamente dicha ley y sobre todo

al derecho subjetivo y qué dice el borrador de decreto que el gobierno colgó en irekia y que tenía vocación

pues dice que tiene como finalidad efectivamente atender estos artículos de la ley tres barra dos mil quince y dice y aquí es donde

que lo hace de acuerdo con la voluntad del legislador con el ritmo gradual que lo ha previsto el legislador y lo hace tomando en consideración

y por lo tanto ya tenemos una primera cuestión de naturaleza jurídica y política porque la regla general es que las normas jurídicas las aprueban las instituciones competentes para ello tratando de

que tienden a orientar determinado orden social sin embargo el derecho transitorio no va dirigido a los particulares sino que va dirigido precisamente a los aplicadores de la ley

el artículo o las disposiciones transitorias tienen naturaleza temporal y pierden su eficacia una vez cumplida la condición a la que están sometidas y he aquí

es convertir en permanente lo que no era más que una situación transitoria es decir que el régimen gradual previsto en la ley que es un régimen transitorio el borrador de decreto

teniendo en cuenta y de forma muy breve que la pensión económica complementaria que sustituye a la adjudicación de una vivienda va a sustituir a la pcv

sus condiciones de acceso y por lo tanto el derecho transitorio que son disposiciones que regulan situaciones existentes es decir pues el tiempo que llevan las personas

entonces estas condiciones son las que se tienen en cuenta

hasta que el reglamento establezca con carácter definitivo y general otra cosa o como pretendía este borrador la misma cosa es decir que fuera

en régimen transitorio y por qué lo hace el gobierno por qué hace esta reglamentación que hace colisionar lo que es un derecho subjetivo anteriormente ya consolidado el derecho a la pensión complementaria de vivienda y lo sustituye por este que tiene unas condiciones más difíciles de acceso bueno pues efectivamente para poder demostrar

dos prestaciones pues obedece a la mala calidad de la ley y por lo tanto no queda otra como así se deduce de la propia enmienda que presenta el partido nacionalista vasco que hay que modificarla hay que modificarla

en los términos en los que está no es posible reglamentar de otro modo cosa con la que estamos en total desacuerdo porque la propia disposición transitoria cuarta

por otra parte la ley de presupuestos para el dos mil dieciséis la ley nueve barra dos mil quince dice por el contrario que hasta que se desarrolle reglamentariamente se utilizará el régimen previsto en la ley dieciocho barra dos mil ocho de la rgi

por qué esta situación de transitoriedad que plantea la ley de presupuestos donde se da preeminencia al sistema de acceso de la pcv ya consolidado

bueno pues de nuevo porque la voluntad del gobierno y del partido que lo sustenta realmente es

anima esta ley y por eso plantean lógicamente

como puede verse claramente el partido nacionalista aboga por eso por la modificación y además mediante la vía de proyecto de ley con todo

por qué no plantea como vimos la semana pasada una reforma exprés de la ley de tasas

si existe alguna dificultar objetiva no no plantea un proyecto de ley es decir

por lo tanto si su vocación fuera resolver los problemas que pueden plantear la ley efectivamente acudiría a una de esas vías que como digo la semana pasada llevamos a cabo aquí y

nada quince minutos en quince minutos se hizo la reforma nada menos que de una ley de tasas por otra parte la ley de vivienda tiene sus pertinentes disposiciones derogatorias

de estas normativas y tampoco en las disposiciones transitorias hay previsión sobre régimen de transición de la pcv a la nueva prestación económica

pero al final de todo qué es lo que nos preocupa a los socialistas lo que nos preocupa es so pretexto a esta cuestión jurídica

es que no tiene política pública de vivienda y que las políticas que alumbra y propone constituyen una carga demasiado onerosa para este gobierno y por lo tanto huye como gato del agua escaldado no quiere efectivamente esta ley porque plantea herramientas plantea instrumentos para llevar a cabo políticas de vivienda y qué es lo que plantea el gobierno

y lo que nosotros planteábamos con la ley de vivienda no era buscar una solución fácil de cualquier manera y mucho menos restringiendo derechos ya adquiridos en todo caso ensancharlos y eso es lo que en todo momento preside el espíritu de la norma a poco que se quiera leer en fin

restricción de derechos o limitación de los ya existentes para nada

claro los recursos de inconstitucionalidad que hablan del derecho subjetivo como en un momento dado

dichas normas pues nos podemos encontrar que la decisión de sustituir la pensión complementaria de vivienda en los términos en los que está actualmente por esta nueva prestación económica que insisto tiene carácter subsidiario aunque parece que para el gobierno tiene un carácter preeminente puede ocurrir

sujeta al derecho subjetivo de la vivienda y sobre el cual gravita la posibilidad de un recurso de inconstitucionalidad qué ocurre sí queda en suspenso qué no hay ningún tipo de prestación entonces bueno

pero hoy de lo que hablamos es de la vocación del gobierno al regular con el primer

ya se plantean serias dudas sobre la vocación de este gobierno para llevar a término ese desarrollo reglamentario en fin con cierta lealtad a los principios y valores que encierra tanto la ley como el acervo asistencial y de protección que tenemos es decir

y por qué creemos que no es necesaria la modificación legislativa en este momento

ni mucho menos para nada una ley que surge en un parlamento

es fruto de voluntades diversas que por supuesto no se armonizan con técnicas jurídicas sino con consensos básicos por eso la ley

lo que plantea son el concierto de voluntades políticas para que haya políticas de vivienda que permitan asignar debidamente estos recursos a la población

y pueda ser atendido por lo tanto nosotros

proposición no de ley en la que le décimos al gobierno que le instamos a asegurar que el desarrollo reglamentario de la ley de vivienda respetará en su integridad el espíritu de la misma que no es otro que el de garantizar el derecho a acceder a la ocupación legal estable de una vivienda digna y adecuada

siempre subsidiariamente y también instamos al gobierno a garantizar que ni el cumplimiento de la ley presupuestaria ni los desarrollos reglamentarios previstos en la ley en cuanto al ejercicio del derecho subjetivo no supondrá ni en requisitos ni en cuantías ningún recorte sobre en lo que la actualidad está regulado para la prestación complementaria de vivienda y en todo caso el decreto que lo desarrolle

cosa que le agradezco enormemente la transacción recoge los aspectos planteados en nuestra iniciativa y también las cuestiones

y trata en todo caso efectivamente de hacer suya la que es la idea inicial de la iniciativa

porque es que le vemos muy remiso por un lado a regular

y le vemos poco proclive también a desarrollar políticas de vivienda por eso aquí

se le insta a que en el plazo de tres meses presente un estudio detallado sobre el impacto de la ley de vivienda y a que en el plazo de tres meses desarrolle un plan para las viviendas

es decir todos estos contenidos de la enmienda de transacción sí que le dan más tarea al gobierno pero entendemos que son las propias de un gobierno que tiene ante sí

que no quiso nunca y ahora entendemos por qué no porque seguramente vaya en contra de sus convicciones ideológicas más profundas seguramente no

a trabajar a funcionar a hacer efectivo todos los aspectos que la ley plantea que no son pocos que no son pocos por eso hubo por nuestra parte también

ciertamente generosa para no hacer más breves los plazos o más inmediatos los plazos de ejecución sin embargo

tiene alto contenido y alto voltaje que necesita un tiempo digamos de puesta en marcha pero para eso hace falta no solo tiempo hace falta también dedicación y entrega

las lleve a cabo y a la vista de este decreto hemos pedido unos informes cuyo plazo para presentación vence mañana si la ficha de este parlamento no me engaña yo espero que

y que han acompañado al gobierno en la elaboración de ese decreto decreto que sigue siendo borrador sabemos que es borrador

alumbra unas intenciones esos informes espero que mañana que es plazo final no sean contestados

para presentarlos porque entendemos que los informes existen todo sea que no los encuentren nada más

sí muchas gracias presidenta buenos días el gobierno vasco se niega

y ante ello este parlamento debe volver a recordar al gobierno vasco que tiene que aplicarla y respetar su espíritu que tiene que respetar el espíritu de la ley de vivienda más allá de los recursos de inconstitucionalidad que merecerían un debate aparte compartimos la justificación

compartimos lo que se dice en la justificación creo que el grupo socialista ha hecho un buen resumen de la situación actual y ha planteado argumentos contundentes para después defender

de acceso a la ocupación legal de una vivienda digna y adecuada y establece que el cumplimiento de este derecho podrá ser reclamado ante el departamento competente en materia de vivienda

asimismo la ley dice que la satisfacción del derecho a la ocupación legal de una vivienda digna y adecuada podrá ser realizada por parte de las administraciones públicas

disposición en régimen de alquiler de una vivienda protegida o de un alojamiento protegido incluso de una vivienda libre en caso de su disponibilidad por causa de programas de intermediación u otros

y en defecto de vivienda o alojamiento y con carácter subsidiario esta satisfacción podrá efectuarse mediante el establecimiento de un sistema de prestaciones económicas

para el establecimiento y aplicación gradual del derecho subjetivo de modo que hasta tanto no se publiquen las disposiciones reglamentarias previstas en el artículo nueve

en concreto tres situaciones recogidas en el texto legal

el decreto dos barra dos mil diez de doce de enero de la prestación complementaria de vivienda señala que la constitución de esta prestación en prestación de derecho la convierte

y es reflejo directo de un objetivo específico a saber articular un sistema de prestaciones económicas de carácter complementario

la ley de veintitrés de diciembre de dos mil ocho para la garantía de ingresos y para inclusión social ampara la prestación complementaria de vivienda

en el marco de la política pública de vivienda medidas análogas o de otra naturaleza se cita también en la justificación del grupo socialista

de vivienda como la ley de presupuestos de veintitrés de diciembre de dos mil quince

el régimen previsto para la prestación complementaria de vivienda en la ley dieciocho barra dos mil ocho de veintitrés de diciembre para la garantía de ingresos y para la inclusión social se mantendrá vigente hasta la entrada en vigor de las disposiciones reglamentarias previstas en el artículo nueve de la ley de vivienda una vez en vigor las disposiciones reglamentarias se dejarán de reconocer nuevas prestaciones complementarias

por tanto tal como señala la justificación es obvio que la prestación complementaria de vivienda se configuró legalmente como un instrumento transitorio hasta contar con otro marco integral en políticas públicas de vivienda la ley de vivienda ofrece la opción de desarrollar los modos de ejercicio del derecho subjetivo

la ley de vivienda establece un régimen transitorio para determinar quienes pueden tener un derecho subjetivo de forma progresiva en tres años siempre y cuando no se produzca la regulación reglamentaria que desarrolle el capítulo once de la misma sobre el derecho

a de tender a su desaparición a través de la asunción por parte del gobierno de su responsabilidad en el desarrollo reglamentario que establezca tanto las condiciones y requisitos

de una vivienda digna y adecuada como del establecimiento con carácter subsidiario de un sistema de prestaciones económicas y a partir de todos estos argumentos las dos

instar al gobierno vasco a asegurar que el desarrollo reglamentario de la ley de vivienda respete en su integridad el espíritu de la misma e instar al gobierno

ni los desarrollos reglamentarios previstos en la ley de vivienda en cuanto al ejercicio del derecho subjetivo a una vivienda digna en su modalidad de prestación económica supondrán

para la prestación complementaria de vivienda compartimos las reivindicaciones del grupo socialista y nosotros a través de nuestra enmienda de totalidad lo que hemos tratado de hacer es complementar esta iniciativa original del grupo socialista

es decir el ciudadano tiene para sí un derecho y al ser este tal significa que esta titularidad está reconocida por el estado entendido este como el conjunto

exige a los sujetos que pretendan accionarlo disfrutarlo es la propia disposición legal en su contexto con las demás del mismo ordenamiento jurídico la que indica y condiciona los requisitos que debe reunir la persona para que por sí misma pueda tener la legitimidad que la ley exige para ejercer su derecho para disfrutar válidamente y efectivamente su derecho la ley de vivienda constituye un hito importante en la profundización de los derechos la consideración como derecho subjetivo del acceso a la ocupación de una vivienda digna y adecuada contribuye a cerrar un círculo que sin temor a equivocarnos constituye en cuanto a la protección social se refiere el derecho a la salud a la educación a una renta de garantía de ingresos y el derecho a la ocupación de una vivienda digna son con toda seguridad los pilares de una sociedad democráticamente avanzada pues bien estos derechos se deben ejercer bajo una proyección positiva desde todas las administraciones públicas ya que son estas las garantes de estos servicios que son estratégicos en una sociedad moderna

el derecho subjetivo de acceso a una vivienda se convierta en el mecanismo principal ni menos aún hacer uso del desarrollo reglamentario de una ley para recortar en derechos sociales que es lo que el gobierno vasco sin ir más lejos pretende

de una vivienda digna y adecuada rompe con el anhelo de igualdad y de justicia que expresó este parlamento a la hora de aprobar de vivienda basándonos en estas argumentaciones nosotros presentamos una proposición no de ley urgente que finalmente no fue admitida a trámite la ley en el artículo nueve punto dos refleja que la prestación económica es una medida subsidiaria únicamente en el caso de que no exista vivienda disponible para satisfacer este derecho subjetivo y no la medida común por la que se resuelve la necesidad de vivienda

ayudas económicas mientras el departamento de vivienda y otros poderes públicos

necesaria una nueva regulación hubiese bastado con la prestación complementaria de vivienda ya existente por otro lado no parece razonable realizar digamos una evolución negativa en el derecho al acceso a la vivienda

el periodo necesario de empadronamiento en un municipio de euskadi para acceder a la condición necesaria para ser beneficiario de la prestación complementaria

en el citado proyecto de decreto se exige una antigüedad mínima de cuatro años de inscripción en el registro de solicitantes de vivienda protegida y alojamientos dotacionales de igual modo este proyecto de decreto recoge en el artículo siete punto unoc

como requisito de acceso a la vivienda requisito que no estaba recogido en la ley y que contraviene en nuestra opinión el espíritu de la misma el desarrollo reglamentario de una ley debe dar un impulso efectivo al propio espíritu de la ley

hacer uso del desarrollo reglamentario justamente para lo contrario para impedir la aplicación de la ley no se puede hacer un uso torticero del contenido de la misma para recortar derechos

el resultado de las demandas realizadas por la ciudadanía vasca con todos estos argumentos nosotros hemos presentado esta enmienda de totalidad que recoge cinco reivindicaciones proponemos instar al gobierno vasco a que en el plazo de tres meses presente un estudio sobre el impacto de la ley de vivienda en la sociedad vasca proponemos instar al gobierno a que en el plazo de tres meses desarrolle un plan para que las viviendas propiedad del gobierno vasco que en la actualidad se encuentran vacías sean destinadas

de una prestación económica que establezca tres años como antigüedad mínima en la condición de demandante exclusivamente de alquiler en el registro correspondiente

instar al gobierno a que para ser inscritos en el registro de demandantes de vivienda de alquiler en ningún caso los requisitos sobre la renta exigibles a los posibles beneficiarios del derecho subjetivo a una vivienda digna puedan ser superiores a los señalados en la ley de garantía de ingresos y para la inclusión social para la obtención

y con todas estas propuestas efectivamente haciendo un sumatorio de las propuestas planteadas por el grupo socialista y por upyd hemos llegado a esta transaccional que como digo recoge todas estas justas reivindicaciones

aplique la ley recuerde cuál es su espíritu lo reconozca y lo aplique cuanto antes esto es básicamente lo que proponemos lo que el gobierno vasco no puede hacer

nada más y gracias especialmente al señor itxaso por la firma de esta transaccional eskerrik asko maneiro jauna

la prestación complementaria de vivienda la pcv es una prestación económica que otorga el gobierno para cubrir las exigencias relacionadas con la necesidad de vivienda o alojamiento que aquellas personas que reciben la renta de garantía de ingresos la famosa rgi

a los efectos del debate de hoy nos interesa destacar la necesidad de cumplir dos requisitos para poder cobrar la pcv

titular de la rgi y dos estar inscrita o haber solicitado la inscripción como solicitante de vivienda de alquiler en el servicio etxebide

dos mil ocho al amparo de las competencias en materia de asistencia social y señalándose expresamente también

en el sistema vasco de garantía de ingresos e inclusión social en tanto no se articulen en el marco de la política

o de otra naturaleza que den cobertura a la misma necesidad de acceso a la vivienda a los colectivos más vulnerables o desfavorecidos

es decir un derecho subjetivo con carácter transitorio en junio del pasado año se aprobó en esta cámara la ley de vivienda

de acceso a la ocupación legal de una vivienda digna y adecuada directamente dirigido también a atender las necesidades de vivienda de los colectivos más desfavorecidos para tener acceso a este derecho se deben cumplir una serie de requisitos que a los efectos del debate también de hoy nos interesa

estar validamente inscrita en el registro de solicitantes de vivienda protegida y alojamientos dotacionales

de la propia ley respecto a determinar quiénes tienen derecho los primeros años de la aplicación de la ley y en ella se exige que los

se señala además que la unidad de convivencia cuente con unos ingresos anuales comprendidos entre determinados límites en función del número de miembros que la componen en estos casos

y solamente cuando una vez reconocido por la administración este derecho subjetivo

solamente entonces digo de modo subsidiario la administración abonará la prestación económica de vivienda es decir que existe una identidad de fines entre la prestación económica de vivienda como materialización del derecho subjetivo de vivienda y la prestación complementaria de vivienda de la renta de garantía de ingresos

el que para ser beneficiario del derecho subjetivo de vivienda se exigen por la ley unos requisitos diferentes a los demandados para los preceptores

al mismo tiempo este parlamento siguiendo una práctica habitual en la propia ley de vivienda faculta al gobierno para dictar normas jurídicas en desarrollo de la misma y cumplimentarla en aquellos aspectos que el legislador juzga como secundarios

de esta potestad reglamentaria otorgada al gobierno en esta materia en este contexto

nuestro grupo ya lo puso de manifiesto durante los trabajos de elaboración del proyecto de ley de vivienda tanto en la fase de ponencia como posteriormente en la aprobación del dictamen en comisión e incluso finalmente en el propio pleno de la aprobación de la ley

va a plantear un conflicto social los perceptores actuales de la pcv que no reúnan los requisitos establecidos en esta ley deberán dejar de percibir las ayudas para el pago del alquiler de las viviendas que ocupan la regulación de este asunto realizado en el documento es tan deficiente que a la entrada en vigor de la ley existirán dos derechos subjetivos uno el propio de esta ley

decíamos también que esta deficiencia supone otro agujero en la seguridad jurídica del ordenamiento aplicable y preguntábamos por

si el uno sustituía al otro o si había algún grado de concurrencia entre ellos

aclarar el régimen aplicable a las situaciones nacidas con el régimen de garantía de ingresos y dar solución a las situaciones que la ley de vivienda provoca en el tránsito entre un sistema y otro

no establece ninguna compatibilidad entre ambos sistemas la disposición adicional únicamente se dedica a manifestar que corresponde al gobierno

se trata de algo que afecta a la facultad de autoorganización de la administración que por cierto es algo que ya está superado por el propio decreto

organizaciónde los departamentos del gobierno pero es que además el asunto se complica sobremanera cuando leemos la disposición derogatoria tercera en la que se dice quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango

por eso ha sido necesario realizar algunas aclaraciones en la ley de presupuestos a las que ya se ha hecho referencia

como decía anteriormente en este contexto de elaboración del decreto regulador del derecho subjetivo

y para resolverlo nos proponen algo que si estuviesemos en un circo se llamaría el más difícil todavía nos proponen que el gobierno en el desarrollo reglamentario de la ley

sin que suponga ni en requisitos ni en cuantía ningún recorte respecto al regulado por la pcv proponen que el gobierno se salte las determinaciones de la propia ley pretenden ustedes que las personas sin permiso temporal de residencia puedan acceder a una vivienda titular de la comunidad autónoma

y nosotros décimos si no están de acuerdo con los requisitos de inscripción en el registro o en el mismo por los ingresos mínimos exigidos por qué los establecieron en la ley por qué pudiendo hacerlo

para ahondar en esta cuestión de determinar el espíritu a nuestro juicio es preciso distinguir entre el fin de la norma la voluntas legis y el fin del legislador

con independencia de su autor del legislador y se denomina por eso mismo interpretación objetiva la segunda al centrarse en la voluntad del legislador se denomina interpretación subjetiva y atiende a lo que el legislador histórico pretendió

parece claramente abonado a la defensa de la interpretación objetiva es decir

si los términos de la ley son claros ha de estarse al sentido gramatical señorías en el caso que hoy debatimos creo que nadie pondrá en duda que la ley de vivienda exige para ser titular del derecho subjetivo de vivienda

y llevar inscrito en el mismo un periodo de al menos cuatro años si el legislador hubiese deseado que ese periodo fuese de tres años pues que lo hubiese establecido así en la propia ley está a nuestro juicio fuera de toda duda que

el reglamento el decreto se subordina total y absolutamente a la ley

existe una relación de jerarquía que no puede ser alterada por el propio reglamento en caso contrario se vulnera el principio de legalidad y todo reglamento que infrinja la

estas cuestiones establecidas en la ley frente a la propuesta inicial y a la enmienda de transacción presentada

que el gobierno elabore un proyecto de ley de modificación de la ley de vivienda para posibilitar

y el sistema de prestación complementaria de vivienda regulado en la ley de garantía de ingresos y asimismo solicitamos que en tanto en cuanto no se produzca esta modificación

se practique de acuerdo con las normas y los principios generales que le son de aplicación en esa tarea reglamentaria

y soluciones de difícil digestión para el funcionamientos normal día a día en el sentido de que puede afectar a los beneficiarios de la prestación complementaria de vivienda o cualquier otra persona que quiera

y para ello proponemos esta fórmula de modificación de la ley de vivienda entendemos que es la más ajustada

la problemática que hoy se nos plantea aquí en este asunto besterik ez eskerrik asko eskerrik asko aldaiturriaga jauna

señora presidenta buenos días a todos bien igual que la semana pasada volvemos a debatir hoy de vivienda

algunos ya avisamos que se iba a producir cuando se aprobó la ley de vivienda y hay un refrán que además lo comentábamos antes que era

vienen estos lodos versa la proposición sobre el desarrollo reglamentario de la ley de vivienda que como digo se aprobó en esta cámara y concretamente del derecho subjetivo de acceso a la ocupación de una vivienda la semana pasada dije y quiero reiterarlo hoy aquí que desde este grupo porque parece que aquí verdad

parecen estar autorizados a hablar de ley de vivienda y solo algunos grupos políticos parece que quieren que exista una ley de vivienda y que están a favor del derecho

y quiero decir que este grupo siempre ha demandado que existiese una ley de vivienda una ley que articulase que se hiciese efectiva ese derecho a contar con una vivienda digna y adecuada porque mire señor maneiro el derecho a una vivienda

el que el estado tenga que los poderes públicos tengan que garantizar una vivienda

viene consagrado en la propia constitución viene consagrado en la propia constitución y nosotros dijimos cuando se aprobó esta ley que teníamos muchas dudas sobre la seguridad jurídica de la misma y sobre el encaje constitucional de alguno de sus preceptos porque esta ley no se ha impugnado porque sea una buena ley como algunos dicen aquí no no se ha impugnado porque muchos de sus preceptos no tienen encaje constitucional y lo dijimos ya en el momento en que esa ley se debatió

que precisamente haga efectivo ese derecho pero que reconozcamos esto no quiere decir que digamos que cualquier ley de vivienda es positiva y se tiene que admitir y ya dijimos que la que se aprobaba aquí con ella no estábamos y usted ha hablado del consenso señor itxaso no se equivoque ustedes no buscaron el consenso porque la proposición de ley que presentaron era una mala copia porque incluso introducía

del proyecto de ley que presentó el grupo socialista pero que como no tenía el gobierno socialista perdón como no tenía en ese momento los votos suficientes

le podía dar que esa ley saliese pero eso ni significa que hubiera consenso en esa ley ni significa que esa ley que salió por mucho que tuviera una mayoría aritmética tuviera una buena ley y en la prueba es la proposición que hoy han tenido que presentar hoy aquí porque esa ley contenía

y mucha demagogia muchos lemas como que parece que es necesario para garantizar el derecho a la vivienda que este sea reconocido como un derecho subjetivo y yo se lo dije entonces y lo quiero volver a reiterar ahora

la cuestión es que se tengan los medios económicos que los poderes públicos tengan los medios económicos suficientes para hacer efectivo ese derecho y ustedes han aprobado los presupuestos este año

y ahora se dice que se haga un estudio sobre el impacto de la ley de vivienda oiga no hubiera sido más

hecho antes de aprobar la ley de vivienda de lo que iba a suponer económicamente aprobar esa ley de vivienda porque fíjense ustedes si eran conscientes de que dependía económicamente de ello que establecen un régimen transitorio oiga un régimen transitorio que lo cifran en tres años

para poder ir aplicando ese derecho y además establecen una serie de requisitos y aquí se habla de esa prestación económica y de la compatibilidad sobre la prestación

y efectivamente y como ha dicho el señor aldaiturriaga aquí ya pusimos de manifiesto que los requisitos eran diferentes para una y otra

y que qué iba a pasar cuando se aprobase esa ley cómo se iban a conjugar las dos porque se pone el primer punto que además dice no no

en que efectivamente hay viviendas vacías y de hecho ha habido otras iniciativas al respecto que pueden estar a disposición de los poderes públicos

pero es que la propia ley se establece que si no hay esas viviendas a disposición de los poderes públicos

si no se está de acuerdo con la prestación económica que no se hubiera puesto que no se hubiera puesto y luego se pone que hay que respetar el espíritu oiga el espíritu

porque en un estado democrático de derecho la jerarquía normativa existe y lo que no se puede hacer es porque ya si lo hicieran si lo hiciera el gobierno

en otros aspectos es decir si el gobierno a la hora de hacer un reglamento y desarrollar una ley estableciese preceptos contrarios

o disposiciones contrarias a las que vienen recogidas en la ley todos pondríamos el grito en el cielo porque evidentemente el espíritu sí pero ya le digo la letra también

por vía de desarrollo reglamentario no se puede transformar en su caso habrá que cambiar la ley pero no se puede transformar

se tendrá que cambiar la ley pero vía desarrollo reglamentario no lo que pasa es que se lo dije este grupo lo dijo cuando se aprobó la ley era una ley que contenía

y de que además acusando a los que no apoyábamos esa ley porque decíamos

un papel lo aguanta todo pero que luego hay que poner los medios económicos para que lo que viene en ese papel pueda ser aplicado bueno pues a los que decíamos eso

y se nos sigue acusando de que realmente nosotros no creemos en el derecho a la vivienda que nosotros no estamos de acuerdo en garantizar una vivienda digna adecuada y accesible a aquel que no tenga recursos económicos y mire no lo que nosotros no estamos dispuestos no lo estuvimos entonces y no lo estamos ahora es a engañar a los vascos a crear falsas expectativas a los vascos a decir que esta ley iba a ser la panacea que iba a resolver todo porque no es así

no es así por mucho que una ley lo diga por mucho que una ley lo diga pero es que encima era una mala ley además de no ser una solución además de ser populista

a la primera de cambio ustedes han tenido que decir que lo que va a hacer el gobierno porque eso se recoge en los preceptos establecidos en la propia ley no lo haga oiga

hubieran puesto tres meses en vez cuatro hubieran puesto otros recursos económicos

pero cuando ustedes se dan cuenta de lo mala que era la ley y de los defectos que tiene la ley dicen ahora que el gobierno reglamentariamente lo desarrolle y salve esos defectos y si no los salva es que no está de acuerdo

un gobierno una vez que la ley aprueba quien la cámara

no tiene más obligación que desarrollarla como así se le mandata en la propia ley

pero tiene que hacer un desarrollo reglamentario sin saltarse la ley sin saltarse la ley y la verdad es que yo se lo dije en su momento esta ley iba a traer

porque había muchas cuestiones que eran inconstitucionales y ahí está había muchas cuestiones como la complementariedad de las dos prestaciones que iban a traer problemas porque de ampliar los derechos se podían ver restringidos y todas esas cuestiones que pusimos de manifiesto en ese momento ahora

a pesar de que todo el debate tiene que ver efectivamente con interpretaciones jurídicas que por cierto aprovecho para decirle señora llanos que sí que claro que

disposición transitoria transitoria y el borrador de decreto lo que plantea es hacer definitivo lo que la ley plantea como transitorio pero yo no me quiero deteneren las cuestiones jurídicas

una posición a explicar una posición política que el pnv no quería esta ley vamos eso creo que

y solamente hace falta recordar algunos episodios emblemáticos como por ejemplo las propias enmiendas que presentó el partido nacionalista vasco bajo contrato o aquella apelación al efecto llamada mundial es decir aterrorizando al mundo mundial sobre los efectos que iba a traer la ley si se aprobaba en esos términos lo que ha encontrado

es que la preocupación que teníamos los que abogábamos por una ley en estos términos o parecidos era que la falta de convicción del gobierno con toda probabilidad podía hacer en esta fase cuando llega la hora del desarrollo reglamentario empezaran a aparecer problemas sin fin problemas sin fin y este es un problema que se ha creado artificialmente porque en ningún momento

se ve abocado inexorablemente a hacer ese borrador del decreto cuando puede hacer otro

de momento y con los términos jurídicos en la mano

el sistema de la pcv tal y como lo hemos conocido hasta ahora y lo que décimos es hombre esa transitoriedad

efectivamente de integrar una prestación en la otra pero lógicamente manteniendo las condiciones las mejores condiciones de la existente no empeorándola porque esa no era la voluntad del legislador y no sé de donde se puede deducir lo contrario

tanto ustedes como el partido nacionalista vasco proponen una modificación yo no seré el que diga que no hace falta modificar porque es que

y el derecho es siempre dinámico es decir no es algo estático está en movimiento y siempre se precisa una revisión

son farragosos pero todos los días aparecen casuísticas y necesidades que plantean

y somos los primeros en aceptar las limitaciones que tiene la ley lógicamente decimos que no es perfecta y décimos que sí que es fruto de consensos de consensos básicos porque usted debió decir muchas cosas señora llanos pero debió ser en una de las contadas ocasiones en la que acudió a ponencia porque a ustedes partido popular el tema de la ley de vivienda

una higa de manera que como digo no estamos ante una cuestión jurídica que si lo fuera tendría también solución y tendría respuesta

lo que estamos es ante la potestad reglamentaria como dice el señor aldaiturriaga y esa potestad reglamentaria constituye

amplia muy amplia ya lo dijo el conde de romanones hagan ustedes las leyes que yo haré lo que salga de lo que rime con mi apellido

y esa es la facultad que tiene el gobierno ha elegido justamente

mayor disturbio la que crea mayor polémica la que parece que nos aboca a un callejón sin salida pero no era inexorable el gobierno podía haber hecho otro borrador de decreto tan es así

probablemente necesitado de correcciones que esperamos que no sean tan cicateras que esperamos que sean las correcciones oportunas

vertiente de prestación económica que insistimos nos parece siempre una medida subsidiaria y aquí parece que se plantea que es la medida principal siga los criterios y los requisitos que se han seguido con la pcv hasta el momento y que no haga un reglamento restrictivo

no creemos que sea fruto de las dificultades que tiene la ley es fruto de las dificultades que tiene el gobierno del partido nacionalista vasco para digerir los términos de esa ley

que no las quiere llevar a cabo y que prefiere quitarse de en medio el asunto de esta manera que a nosotros nos parece que es contradictoria con lo que deben de ser las políticas públicas de vivienda
gracias señor maneiro por su disposición eskerrik asko itxaso jauna

llanos ha dado en la clave cuando dice que

definir esta como una buena ley porque hoy en día queda demostrado que no hay que pueda proteger derechos fundamentales

encaje en el marco constitucional solo hay que ver los recursos que está poniendo

estatal y lo que está decidiendo el tribunal constitucional para ver que cada vez es más difícil proteger los derechos básicos de la ciudadanía y tener encaje en la constitución lo mejor que podemos hacer con la constitución nos lo han dicho desde cataluña es quemarla para calentarnos con ella

a partir de aquí voy a decir cuál es el sentido de nuestro voto y el sentido de nuestro voto con la enmienda transaccional

va a ser favorable por una razón que creemos que si se aprueba hoy esta propuesta

el gobierno cumple lo que dice esa propuesta que esa es otra seguramente ese desarrollo reglamentario se hará protegiendo los derechos que hoy en día existen para muchas personas dentro de la prestación complementaria de vivienda y el mal será menor aun así

y por eso registramos ayer una propuesta de ley que hay que cambiar la disposición adicional segunda de la ley no por la propia disposición adicional segunda de la ley sino por el desarrollo que luego ha atenido en la ley de presupuestos y sobre todo viendo el reglamento del gobierno

porque pensamos que a día de hoy todavía tienen que convivir no ser compatibles pero tienen que convivir la prestación complementaria de vivienda que se regula en base a la ley de garantía de ingresos y la prestación económica subsidiaria que se recoge en la ley de vivienda porque tiene su sentido como he dicho antes si hacemos frente

más vulnerables no haya dos una por la vía social y otra por la vía de vivienda sino que haya una pero hoy en día todavía eso no se da y según cómo se desarrolle

es cercenar derechos que es lo que se deja entrever en el reglamento del gobierno por lo tanto lo queremos dejar claro en la ley y en la disposición adicional segunda proponiendo que sea el departamento de vivienda quien regule la prestación subsidiaria de esa ley

por el departamento de políticas sociales y dentro del marco

de ingresos la prestación complementaria de vivienda y ya veremos en el transcurso de la ley y en el desarrollo de la ley que da eso de sí y así además conseguimos otro objetivo que es no dejar en manos del gobierno el regular

la pcv la prestación complementaria de vivienda porque hemos visto la nula sensibilidad social no del gobierno solo sino del partido que sustenta

sino esta misma semana con la medida que ha anunciado en gipuzkoa quitándole

no queremos dejar en manos de ese partido también regular la prestación complementaria de vivienda

en la ley que tiene que seguir regulándose como está hoy en día por eso

de la enmienda transaccional y defenderemos la necesidad de hacer una modificación una modificación que para nosotros tiene que ser muy sencilla y de lectura única

que la pcv tiene que seguir regulándose como hasta hoy en día eskerrik asko maeztu jauna

en el corto plazo ningún tipo de modificación legal que afecte a la ley de vivienda ha sido recientemente aprobada y por lo tanto nuestro interés es que pueda efectivamente desarrollarse y aplicarse en sus justos términos esto es lo que pretendemos en el corto plazo y por lo tanto

la ley porque la ley contiene errores o es perceptible nos parece un inmenso error y nosotros no vamos a entrar en ningún caso en ese juego se trata efectivamente como en todo lo demás de voluntad política de que el gobierno vasco

y la aplique cuanto antes y en beneficio del conjunto de la ciudadanía ese es por tanto nuestro propósito y seguirá siendo

siempre que se debata algo relacionado con la ley de vivienda que se encuentra

el portavoz del grupo nacionalistas vascos señalaba en su intervención que la existencia de dos derechos subjetivos nos lleva

con estas palabras yo creo que el conflicto social o al conflicto social se llega precisamente cuando no hay derechos que sean aplicables al conjunto de la ciudadanía yo creo que al conflicto social se llega cuando se producen desahucios yo creo que al conflicto

como consecuencia de que no tienen los recursos económicos suficientes para acceder a una vivienda digna y adecuada yo creo que al conflicto social se llega cuando hay ciudadanos que no pueden llegar ese es el conflicto social que tenemos que enfrentar no hay conflicto social como consecuencia de que existan dos derechos subjetivos

a la prestación complementaria de vivienda y el derecho subjetivo a disfrutar de una vivienda digna y adecuada es justo lo contrario es la ausencia en su caso de derechos subjetivos los que llevan al conflicto social

es no aplicar la ley o aplicar lo menos posible de ella por su parte la señora llanos decía que parece que solo algunos grupos quieren una ley de vivienda

esta ley de vivienda y lo que parece claro es que solo algunos grupos queremos una ley de vivienda que reconozca el derecho subjetivo a disfrutar de una vivienda digna y adecuada porque ustedes votaron en contra de esa ley

o fuera mejorable o tuviera determinados errores que existen según ustedes sino porque estaban en contra de la propia filosofía de la ley de vivienda estaban en contra de garantizar a los ciudadanos un lugar habitar y por eso votaron en contra más allá de que ahora aprovechen las dudas que algunos otros grupos siembran sobre esta ley para plantear esa cuestión y decir sí ustedes estaban en contra pero en fin ya lo decíamos nosotros que esta ley podría traer problemas no viene del gobierno vasco y de su falta de voluntad en desarrollar como corresponde esta ley porque ciertamente la iniciativa del grupo socialista y la iniciativa de upyd que se registró en su momento no surge porque la ley de vivienda contenga errores sino porque es manifiesta la voluntad del gobierno vasco de no respetar su espíritu

y como es evidente lo que se trae aquí es una iniciativa para recordarles oigan

ya hicimos el trabajo correspondiente en la ponencia y en la comisión se aprobó esa ley y por lo tanto lo que corresponde es aplicarla con rigor por lo tanto ustedes no se opusieron a la ley de vivienda porque contuviera errores sino porque se oponían y se oponen

un derecho subjetivo el partido nacionalista vasco el gobierno vasco podemos recordarlo hizo todo lo posible para que la ley adelante hizo todo lo posible durante la tramitación de la misma y ahora también habló de que esta ley en fin provocaría un efecto de llamada mundial habló de que la aprobación de esta ley de vivienda iba

graves recortes sociales habló el gobierno vasco en su momento de que la aprobación de esta ley de vivienda iba a traer gravísimos problemas presupuestarios era todo falso era todo mentira era cuestión de voluntad política y a día de hoy podemos recordarlo hay miles de pisos vacíos en manos de la administración

esto hay que cambiar y tenemos el instrumento que es la ley de vivienda lo que falta es

voluntad política y evidentemente también recursos presupuestarios

evidentemente se garantizan con el dinero público y hay varias opciones destinar el dinero público a lo realmente importante a la salud

los recursos públicos a otros menesteres es cuestión de voluntad política recientemente según los datos de los que disponemos el gobierno

un gobierno de una institución vasca en concreto de la diputación foral de gipuzkoa

condonó deudas millónarias a un equipo de fútbol decenas de millónes de euros eso es derrochar dinero público si en lugar de tomar esas decisiones

no habría ningún problema es cuestión efectivamente de voluntad política

en la idea de que es una mala ley de que contiene errores no es cuestión de voluntad política si se quiere se puede y es evidentemente prioritario garantizar a la ciudadanía vasca un lugar donde poder dormir todas las noches creo que esto es algo prioritario debería serlo al menos y para nosotros lo es

eskerrik asko mahaiburu andrea bueno en primer lugar a la vista del desarrollo

diremos que vamos a solicitar la votación separada por puntos los puntos

porque estamos de acuerdo en que se dé prioridad a la ubicación de las familias unidades convivenciales

y también estamos de acuerdo con el punto siete en el que en plazo de tres meses

en el marco de la ley de vivienda que como se ha dicho por activa y por pasiva

señor itxaso no se sacuda las pulgas con este asunto el problema reside en digamos en la redacción que dieron ustedes a ese texto

en alguna medida de remisión al gobierno en esta materia porque ahí está la clave en las relaciones de la potestad legislativa

digamos el poder normativo entre el parlamento y el gobierno y en este caso la ley de vivienda que se faculta al gobierno para determinar los criterios para implantar el derecho subjetivo y se deja al mismo su progresiva ampliación se faculta para en la terminación en antigüedad mínima

y sobre los problemas sin fin señor itxaso que se plantea con esta normativa que usted ha citado he decirle que según

y la verdad señor itxaso que para una vez que el legislador se atreve a introducir algo al respecto que es

lo dispuesto en la disposición transitoria pues la verdad es que ha liado un enorme ha creado un enorme problema

que este gobierno practica recortes en esta materia y yo creo queda de manifiesto que la prestación complementaria de vivienda aprobada por este grupo

de ayuda para alquiler de vivienda de modo más amplio que el derecho subjetivo a la vivienda que regulado por ustedes en su propuesta el derecho subjetivo

lo dijimos en su momento y lo décimos ahora el problema no es el borrador del decreto el problema es la ley de vivienda

que quienes le acusan al gobierno de practicar estos recortes sean los primeros recortadores

según mis noticias tampoco no ha habido ninguna persona que se haya acogido a esas medidas establecidas en la ley crearon falsas expectativas y ahora se pone de manifiesto también que han puesto en un serio aprieto a los perceptores de la pcv porque muchos de estos perceptores no pueden cumplir como digo los requisitos exigidos en la ley de vivienda

a nuestro juicio es modificar la ley porque la interpretación de las mismas no faculta para su modificación tal como se plantea aquí y sobre

en la redacción de la ley en los textos por tanto lo primero es leer lo escrito si el término es claro ha de estarse a sentido gramatical estar válidamente inscrito en el registro dice el artículo nueve y con una antigüedad mínima de cuatro años insisto dice la transitoria cuarta

de la ley sería necesario incorporar el texto legal

y a propósito de la voluntad del legislador si nos atenemos a los antecedentes de la ley también

cuando fue requerido al respecto por nuestro grupo ese callarse ese hacer mutis por el foro

podemos hablar de torpeza del legislador que se manifiesta en una

en el no establecimiento de un régimen transitorio para la prestación complementaria de vivienda

normativa importantísima que lesiona el principio de seguridad jurídica fíjense ustedes el juego que está dando esta ley de vivienda que en apenas seis meses desde su entrada en vigor tenemos ya

a ver en qué termina se han producido ya dos modificaciones una la efectuada en la ley de presupuestos y otra la semana pasada en la modificación de la ley de tasas y precios públicos

que se avecina por lo que se anuncia por el señor maeztu que en ese sentido viene a coincidir con nuestra postura que es necesario modificar la ley no vale con el desarrollo reglamentario o sea que en ese sentido pónganse ustedes de acuerdo

el problema insisto no reside en el borrador del decreto que está elaborando el gobierno el problema reside la redacción efectuada por la ley de vivienda y si se quieren modificar estas políticas

este asunto se pueden verter en esta tribuna

cuando la demagogia lo hacen determinados partidos

muy sociales o sea y en cambio el resto de los grupos verdad no nos interesa nada

cumplimentar los derechos sociales mire señor maeztu no es porque

y nosotros lo dijimos aquí esta ley afectaba al estatuto de la propiedad que competencialmente y en la constitución dice que tiene que ser regulado por el estado punto ya lo dijimos o sea no es cuestión de que recoja un derecho o no no es

es cuestión de que se establece una serie de competencias que son reservadas al estado y algunas de las reguladas en esa ley así lo era mire señor maneiro

no dijo solo porque estaba mal hecha que se oponía a la ley no es verdad que dijimos que no era necesario

para la satisfacción del derecho a la vivienda que se le catalogase como derecho subjetivo pero no solamente lo decíamos nosotros es que

en los propios informes que acompañaban al proyecto de ley que después se transformó en la proposición de ley así lo establecía porque la cuestión no es poner en un papel que hay un derecho subjetivo que puede ser reclamado jurisdiccionalmente la cuestión es que económicamente eso se puede hacer

y hay que decir claramente de dónde se va a quitar

para tener más recursos económicos para poder garantizar ese derecho si no

consagrado en un precepto legal que esté no se podrá hacer efectivo y yo estoy de acuerdo con usted en que ese derecho debe de hacerse o debe materializarse en primer lugar entregando las viviendas vacías que tiene el propio gobierno o que tienen las propias instituciones públicas de acuerdo

en desvincular la prestación complementaria de vivienda de la rgi porque es verdad que hay personas que pueden tener recursos suficientes y no tener

no pueden garantizar su derecho a la vivienda y por ello debieran de estar separadas

dos y mire señor itxaso mire yo no se si fui a cuatro a seis se me debieron hacer muy largas porque hacíamos debates verdad

profundos de cuestiones que vamos le dábamos unas vueltas filosóficas que hacíamos simposios más que debates de ponencias yo solo

las pocas a las que fui verdad y es que cada vez que se proponía una enmienda se trataba una enmienda de este grupo o del grupo nacionalista vasco

a ver qué hacía y si le daba el plácet usted votaba que sí y no le daba el plácet pues votaba que no a la enmienda verdad

no le importaba contradecir el propio espíritu de la iniciativa que ustedes habían presentado porque ustedes lo único que querían usted que hablaba aquí el otro día a propósito de las cláusulas sociales

que es que ustedes habían propuesto una iniciativa

vía enmienda del grupo eh bildu a la que originalmente salió y ese es el consenso que ustedes buscaban y usted habla de política pública de vivienda

en que puede hacerlo efectivamente mucho mejor pero y la que

qué era vender determinadas viviendas a un fondo acabar la legislatura sin una ley de vivienda porque la que presentaban no tenía el consenso suficiente

correos que hemos recibido a propósito se habla de la prestación complementaria de vivienda y de lo escaso que resulta doscientos cincuenta euros

ustedes señores socialistas ustedes qué pasa que

y de mucha de la ineficacia y de la ineficiencia de este gobierno ustedes son absolutamente corresponsables

cocina central goñi sl cocina central magui sl

las arenas sa gastronomía cantábrica sl eta gastronomía vasca

presidenta proponemos de la mano del partido popular la constitución de una comisión de investigación que investigue políticamente el fraude de los comedores escolares y en concreto todo el proceso que culmina con la contratación de los servicios de comedores escolares de gestión directa del gobierno vasco

de la iniciativa la autoridad vasca de la competencia por resolución de fecha cuatro de febrero de dos mil dieciséis sanciona con un importe de dieciocho millónes de euros a las ocho empresas señaladas por haber llevado a cabo al menos

una práctica concertada de reparto del mercado de la prestación de los servicios de comedores escolares de gestión directa del gobierno vasco es decir por haber actuado como

en concreto la autoridad vasca de la competencia impone una serie de multas que van del medio millón de euros a en algún caso más de seis millónes

señaladas la autoridad vasca de la competencia declara en su resolución

muy grave de la ley de defensa de la competencia la cual prohíbe cualquier práctica concertada entre empresas que tenga por objeto o por defecto restringir la competencia en el mercado el departamento de educación convocó licitaciones para la prestación de servicios de comedores desde dos mil tres

estas licitaciones se realizan por un procedimiento en dos fases en la primera las empresas acreditan su capacidad para prestar el servicio en la segunda

de los lotes respecto a la primera fase la empresa encargada de acreditar y conceder la homologación fue durante largos años laboratorios araba el asesor privado de muchas de las empresas homologadas además esta empresa no está inscrita en el registro de empresas certificadoras autorizadas para auditar los sistemas de calidad al parecer esta empresa únicamente está autorizada para realizar análisis de alimentos sin que cumpliese los requisitos que serian exigibles para conceder unas homologaciones que eran una condición imprescindible para obtener la contratación del departamento de educación del gobierno vasco las personas que verificaban y visitaban las instalaciones para efectuar la homologación de las empresas eran

del departamento de educación y el segundo en calidad de director de laboratorios araba laboratorios araba y el técnico del departamento de educación sin cualificación acreditada eran los que determinaban cuáles eran las empresas que podían competir para obtener

siendo finalmente elegidas siempre las mismas empresas la autoridad vasca de la competencia considera acreditada la práctica concertada por las empresas mencionadas para el reparto entre las mismas de la prestación de comedores escolares la autoridad vasca de la competencia considera demostrado que durante al menos diez años las empresas sancionadas renunciaron a competir

por medio de una pauta orquestada de presentación de ofertas con el objetivo de conseguir un reparto de lotes así

de comedores en el mismo lote y a un precio alterado al alza de tal forma que las empresas sancionadas las únicas en obtener primero la homologación que les permitía acceder a la contratación y concertar después el reparto de los recursos públicos esta práctica ha podido suponer un quebranto de más de doscientos millónes

quebranto de dinero público para la administración y por tanto para el conjunto de los ciudadanos por mucho que el gobierno vasco y en concreto la consejera de educación

la perjudicada es únicamente la administración pretendiendo dejar al margen a los ciudadanos del perjuicio sufrido últimos páganos de todo este escándalo

extraordinario para las empresas resulta poco probable o directamente imposible o difícilmente creíble que todo esto haya podido ocurrir sin el consentimiento la participación

o la pasividad de los responsables políticos de la administración del dinero público esto es lo que queremos investigar a través de la comisión de investigación que proponemos crear y poner en marcha al objeto de depurar

que correspondan es cierto que este asunto lo hemos debatido recientemente en este parlamento

en nuestra opinión un paso necesario en concreto como digo crear esta comisión de investigación no vemos que haya argumentos de ningún tipo para oponerse

el pasado día tres de marzo se aprobó una transaccional firmada por nacionalistas vascos socialistas vascos y eh bildu en relación a este tema en ella el parlamento vasco instó al gobierno vasco a poner en conocimiento de la fiscalía la resolución del expediente de la autoridad vasca de la competencia

penales a estudiar si se ha producido un daño patrimonial y los servicios jurídicos inicien cuantas acciones legales sean necesarias para resarcir a las arcas públicas de los daños y perjuicios causados y a intensificar los trabajos con los diferentes agentes

analicen y decidan los pasos a dar con el objetivo último de adecuar el modelo de gestión de los comedores de modo que en su caso cada centro público pueda llegar a elegir

parlamentario digamos insuficiente queremos abrir y es lo que proponemos una comisión de investigación para determinar las responsabilidades políticas

y otra cosa son las responsabilidades políticas lo que pretendemos evidentemente es crear una comisión que detecte las responsabilidades políticas

en todo lo que tiene que ver con lo sucedido en este tema en los últimos años el escándalo afecta a la mayor contrata del departamento de educación del gobierno vasco es extraño que nadie supiera nada o que no se percibiera esta forma tramposa de actuar por parte de las empresas concernidas lo que proponemos en todo caso es que se investigue para saber si efectivamente se conocía esto y se prefirió no hacer nada o si simplemente lo responsables políticos no estuvieron a la altura

tanto en un caso como en otro entendemos nosotros que puede haber

o por omisión hablamos de la mayor multa nunca impuesta por la autoridad vasca de la competencia hablamos de un quebranto de dinero público de más de doscientos millónes de euros frente a las declaraciones de la consejera de educación insistiendo en que las familias no se han visto

autoridad vasca de la competencia señala que es difícilmente sostenible que si ha habido un sobreprecio no haya repercutido

a las familias independientemente de que esta forma de proceder se vaya a corregir en el futuro independientemente de que estas cosas no puedan volver a ocurrir

de estas prácticas fraudulentas anteriormente señaladas no queremos prejuzgar a nadie sino lo que queremos es investigar

todas las responsabilidades políticas puesto que supuestamente todos los grupos estamos de acuerdo en que tiene que haber la máxima transparencia entiendo yo que no hay razones de peso para votar en contra de esta iniciativa pero en fin es posible que esto

pueda ocurrir en el día de hoy en el caso de que haya grupos que voten en contra de esta iniciativa tendrán que explicar a la ciudadanía por qué no quieren que se sepa la verdad de lo que ha ocurrido en este gravísimo asunto

muchas gracias señora presidenta y nuevamente

un asunto que creemos que es de la máxima importancia el fraude que destapó una empresa solicitante que vio como concurso tras concurso eran las mismas empresas las que se llevaban

de la contratación de los comedores escolares fraude que fue además también corroborado por la autoridad vasca de la competencia que puso

pero una multa que resulta muy barata a las empresas porque las empresas que ya en la presentación de las mantenían un beneficio

importante además aplicaban un sobrecoste que les producía un beneficio añadido de más de doscientos millónes de euros

de más de doscientos millónes de euros le aplicas una multa de menos del diez por ciento pues les va a seguir interesando

o todos los cárteles que puedan en esta contrata y en otra porque se ha visto que aquí la concertación de empresas sale gratis

de una manera decidida está empeñado en mirar para otro lado y cuando ha tenido la oportunidad de demostrar que no tenía nada que ver caso de fraude y de corrupción pues ha decidido modificar las bases del concurso para cambiándolas seguir beneficiando a las mismas empresas promover

para que sean cuatro empresas las que se lleven los dieciocho lotes de los comedores escolares en concreto una empresa señorías

en los últimos cinco años donde hemos traído un montón de veces aquí este asunto el pnv que ha decidido meter mano aquí en otoño cambiando las bases del concurso ha decidido que para diversificar el asunto y que no se lleven los diez lotes siempre las mismas siete empresas

quién se lleva los dieciocho lotes pues las mismas cuatro empresas esta vez ya son solo cuatro

muchas veces tienen el cien por ciento de capital pertenecen al mismo grupo

tres nombres distintos son la misma empresa oiga pues la misma empresa

llevarse de los dieciocho nueve lotes la mitad de la contratación de los comedores escolares de nuestra comunidad se lo lleva una sola empresa

y denunciada por fraude y resulta que hemos decidido darle para los próximos cuatro años la mitad de la contrata

del país vasco y las otras tres amigas de esta empresa con la que han venido haciendo tratos para repartirse el resto de los lotes se llevan tres cada una

llevándose los lotes a precio máximo y aplicando un sobre coste del treinta por ciento pues se llevan tres lotes cada una así que cuatro empresas se han llevado

luego estamos ante un fraude millónario donde los técnicos como recordaba el señor maneiro que supervisaban el proceso durante todos estos años dieciocho años que es que la autoridad de la competencia ha analizado los últimos diez

y las mismas empresas se llevaban la pasta desde hace dieciocho años claro es verdad que los últimos años mucha más porque es verdad que los últimos años se ha extendido el servicio de comedores escolares prácticamente se ha generalizado

dieciocho años son las mismas empresas las que se llevan toda la contratación de comedores escolares y resulta que el sistema era el mismo a pesar de que siempre eran las mismas las que se llevaban a precio máximo los lotes

eran los mismos laboratorios araba casualmente una empresa que asesoraba

a estas otras que luego se llevaban las contrataciones resulta que

y resulta que los responsables políticos de la mayor contrata del departamento pues ni la miraba ellos se dedican a otras cosas los responsables al final están en otros asuntos importantes para qué se van a fijar

la mayor contratación del departamento pues que se la sigan llevando los mismos oiga que están denunciando que son siempre las mismas y además nos está saliendo muy caro un treinta por ciento más

llega un gobierno llega otro consejero oiga y aquí no hay que dudar de nadie pero efectivamente a ver si es que

a ver si ahora vamos a tener la culpa nosotros de que es que apoyamos

es que nos dice la consejera que a ver si la responsabilidad de esto de los comedores es del pp

porque aquí se ha perjudicado claro por no haber mirado antes claro ellos no tenían que mirar

pero por si acaso el pnv ha decidido que se lo sigan llevando los mismos los próximos cuatro años y bueno ya vamos a analizar bueno si le hacemos un favor a bildu

y decidimos que en algunas ikastolas pues les compren los puerros y las hortalizas a no sé qué caseríos

de que bueno vamos a hacer un sistema mixto para que sean las mismas empresas para que se sigan llevando doscientos millónes pero bueno así repartimos un poco oiga y que la comida se la compren a algunos caseros de confianza

que nadie proteste y esto es señora consejera ya que está aquí

esto es una auténtica tomadura de pelo porque es que ayer entraron en la casa de un alcalde

oiga el alcalde esta mañana en una radio decía yo tengo un piso de ciento veinte metros entraron

trece con cascos ametralladoras escudos estábamos mi mujer y yo y entraron a registrar el piso

porque es que dicen que hace no sé cuántos años hay una denuncia de que se dio una

oiga y aquí no digo que le entren a usted en casa con cascos

es que aquí estamos hablando de un fraude porque es que se benefició un señor en granada

oiga es que aquí se ha estado beneficiando en esto que hemos mirado

no miramos vamos a ponernos a mirar más cosas aquí se ha estado beneficiando a las mismas empresas con más de doscientos millónes de euros

se ha modificado el sistema de contratación para qué

para hacer un traje a medida y le vamos a explicar por qué ya repetir los argumentos del señor maneiro

de que es imposible que esto suceda sin la connivencia de la administración de que efectivamente aquí ha habido un quebranto a las arcas públicas de que no se ha perjudicado solo a la administración de que se ha perjudicado al conjunto de la sociedad que es de donde salen

todos esos recursos efectivamente yo creo que es importante que sepamos qué ha hecho el pnv

que necesitamos una comisión de investigación para poner luz y para llegar hasta el final y para saber si ustedes

cuando hemos analizado qué han hecho ustedes para cambiar el sistema y que no se produzca ese fraude hemos visto que lo que han cambiado realmente son una serie de cuestiones que se las vamos a decir aquí para que algunos parlamentarios

han cambiado para que en vez de laboratorios araba que era una cosa de chiste que durante dieciocho años eran los que decidían qué empresas podían licitar y qué empresas no bueno pues ahora lo hace aenor que es una cosa de más prestigio pero aenor que le ponen allí para hacer el filtro le han dicho oiga

mire tienen que decidir a ver qué empresas pasan el filtro de la contratación y bueno y esto con qué criterios bueno pues con estos criterios estas son las bases

bueno ahora en vez de diez lotes dieciocho vamos a repartir y entonces para que haya una libre concurrencia que haya dos empresas distintas

once trece catorce quince y diecisiete solo puja una empresa la misma empresa bueno con dos nombres distintos la misma empresa oiga y se adjudica

su propia modificación y en el diez solo participa una empresa y entonces para disimular dice no este el diez no lo vamos a adjudicar

y entonces dicen y entonces quién lo hace ah pues la que lo hacía antes o sea la que se ha presentado y entonces lo sigue haciendo la misma entonces ausolan igual hay que decir los nombres de las empresas pero bueno están en la presentación para los medios de comunicación ya saben que lo tienen en la propuesta

se ha llevado cinco lotes señora consejera presentándose como única empresa y usted misma

no se podía aceptar que esta vez se limitaba esa posibilidad para

pero es que luego se ha presentado en otros más con amigos con empresas amigas para qué para que el final se lleven los cuatro el mismo lote y qué le han dicho a aenor que además

que luego no han hecho cumplir bueno pues que para

había que exigir una facturación determinada pues tan alta tan alta que prácticamente solo esas cuatro empresas pueden asegurar esa facturación en catering

el noventa por ciento de su facturación se lo deben a la contratación

gracias a la contratación del departamento tienen esa millónada de facturación claro ninguna otra empresa de nuestra comunidad tiene esa facturación para poder aportar en los lotes

hacen es un planteamiento que permite que estas empresas se sigan llevando los lotes a los precios máximos y además

máxima transparencia aquí el que quiera apuntarse a estos lotes nos tiene que decir con antelación quién es y a qué lote va para que las empresas que se solían llevando crudo hasta ahora

siempre están acostumbradas a pujar a precio máximo oiga y no vamos a hacerlo a sobre cerrado no no aquí

sido acusadas de fraude vamos a darles además la ventaja de que en los lotes en los que participan si viene alguien nuevo a competir con ellas no no queremos saber quién y a qué lote oiga y nos encontramos que justo en el lote donde se encontraron un competidor las mismas empresas que pujaban a dos coma setenta y seis

en los límites máximos de precio resulta que justo en el lote donde se presentaba un incauto a tratar de hacerles la competencia en esa ausolan esta que se lleva la mitad de la contratación decide que en vez de presentar un sobre a dos coma setenta y ocho dos coma setenta y nueve que es a lo que se lo suele llevar en esa que tiene competencia lo presenta a dos coma veintidós qué casualidad

pues porque las bases nuevas del gobierno vasco han decidido que aquí para competir con estos cuatro haya que decir quién viene y a qué lote va a competir

en el precio acierten en la bajada para seguir llevándose la contratación

después de no sé cuántas explicaciones ya trato de ser didáctico para que cada uno nos vayamos enterando de qué va esto usted nos sigue repitiendo usted aquí no tiene nada que decir oiga la culpa es de los parlamentarios que no lo miraron durante dieciocho años aquí ha habido otros consejeros oiga la culpa será del psoe

oiga no aquí la responsabilidad sobre todo es de quienes conociendo

y eso viene de esta legislatura señora consejera esta legislatura es cuando hemos conocido que de verdad aquí hay pruebas de que esto es un fraude de tomo y lomo que aquí podemos estar hablando de responsabilidades políticas sino penales y que a sabiendo de eso

una sentencia en firme de la autoridad de la competencia y que a sabiendas de eso no

el psoe que pasó por allí y no levantó ninguna alfombra en cuatro años oiga no

modifican este planteamiento modifican el concurso para que se lo lleven los mismos y además para que se lo lleven los mismos que incluso incumpliendo sus propias bases esas que acaban de modificar a ustedes

ustedes se lo siguen entregando a las mismas cuatro empresas y nosotros queremos saber a través de una comisión de investigación por qué por qué ustedes han decidido que a pesar de todo este lío que además mediáticamente a ustedes les afecta por qué siguen ustedes interesados

que se sigan beneficiándose de toda esta millónada que entregamos

que se sigan beneficiando a pesar del desgaste las mismas cuatro empresas

ustedes nos tienen que explicar por qué están empeñados en seguir beneficiando a las mismas empresas señora consejera nada más y muchas gracias

gracias presidenta bien de alguna manera como se ha dicho antes el debate que tenemos hoy

viene muy determinado por la discusión sobre el mismo asunto que ya tuvimos en el pleno del pasado tres de marzo la posición de nuestro grupo sobre las prácticas de reparto del mercado

las empresas que suministran los menús de los comedores de gestión directa de los centros públicos de enseñanza

desde el tres de marzo hasta acá nuestro grupo ha tenido siempre una disposición favorable a la creación de comisiones de investigación en esta cámara cuando ha habido motivos claros que la justificaran hemos sido los impulsores de la mayoría de las que se han puesto en marcha y hemos apoyado a las demás en esta legislatura

en esta ocasión sin embargo no vamos a respaldar la iniciativa del grupo popular y upyd y no porque quitemos

y los beneficios ilícitos que ha podido suponer para las empresas concertadas si no lo hacemos es porque consideramos que los trabajos de una comisión parlamentaria de investigación

a los puntos que ya se aprobaron en esta cámara el tres de marzo sin hablar de que esta comisión sería prácticamente inoperativa por el poco o poquísimo tiempo que le puede quedar según los casos a esta legislatura en la que estamos

sería depurar cuantas responsabilidades corresponden en el ámbito de la investigación parlamentaria que son evidentemente las que afectarían a la administración pues bien el órgano especializado al que se hace repetidas referencias en todos los discursos

y ha sancionado con severidad a los ocho empresas por hacer cártel también ha señalado expresamente algo que se le ha olvidado

de los anteriores que no ha aparecido indicio alguno de complicidad o favorecimiento de las conductas penalizadas por parte de la administración educativa aquí como en todos los casos cuando se lee algo hay que leer el texto completo para no tratar de inducir a error o manipular las informaciones no se ha detectado trazo de favor o irregularidad alguna en los procesos de contratación y adjudicación

el propio informe de la autoridad vasca de la competencia por lo tanto si la autoridad vasca de la competencia con la especialización los medios y el tiempo que le ha dedicado no ha llegado a apuntar algún tipo de responsabilidad no digamos ya de connivencia en los departamentos de educación que convocaba los concursos o en el órgano

si tampoco encontraron irregularidades los tribunales de justicia que también estudiaron los recursos de la empresa que denunció el caso por haber sido excluida de los concursos

más allá esto no significa que este parlamento y sus miembros nos tengamos que quedar de brazos cruzados ante unas prácticas colusorias que afectan a un servicio que presta directamente el gobierno vasco y en un área muy sensible como es la alimentación

en absoluto porque la resolución de la autoridad vasca de la competencia nos ha hecho ver que las actuales normas de contratación pública que son cada vez más estrictas y garantistas

al concepto de la competencia es decir la posibilidad de acuerdos en la sombra de las empresas que concursan a un servicio público para sacar ventaja

no solo perjudican a las empresas que puedan verse excluidas por un reparto del mercado sino que también puedan afectar a quienes pagan por ese servicio un precio

en este caso la administración y las familias que tienen que cubrir el coste de los menús servidos y precisamente por no quedarnos de brazos cruzados hace un mes

acordamos con el grupo nacionalista y el grupo de eh bildu instar al gobierno

por la autoridad vasca de la competencia para que analice si las conductas que este órgano considera probadas

tienen además responsabilidades punibles de otro tipo como dije entonces para que no nos quedemos en el terreno de las sospechas

resolución por cierto que creo que no tiene precedentes en este parlamento en otras palabras

al repartirse el mercado sin pujar en precios para hacerse con los lotes a concurso

han incurrido las ocho empresas adjudicatarias en otras conductas ilícitas que lo valore quien tiene capacidad y criterio para hacerlo que es la fiscalía

otro tipo de responsabilidades no apreciadas hasta el momento siempre podrá esta cámara tomar cartas en el asunto esta misma semana según se nos ha dicho los servicios jurídicos del gobierno vasco han trasladado a la fiscalía del país vasco la resolución del expediente seis barra dos mil trece de la competencia tal como se instó

el tres de marzo de modo que la fiscalía pueda valorar también si se ha producido un daño patrimonial punible por la concertación de precios que afectarían a las familias que pagan el sesenta y cinco por ciento del precio fijado para el menú escolar

restante se está estudiando también la posibilidad de introducir en las condiciones de contratos cláusulas destinadas a garantizar la competencia entre las empresas concurrentes como sugiere la propia autoridad vasca de la competencia y por otro lado estamos esperando y aprovechamos para recordárselo al gobierno que monte en la que todos los sectores implicados puedan estudiar la viabilidad o no y en qué condiciones de aplicar otras formas de gestión de los comedores de los colegios eso es exactamente lo que se acordó hace un mes sobre la cuestión

son bastante más efectivos para el fin que se pretende que crear una comisión de investigación que yo entiendo y comparto que ustedes planteen desde el punto de vista político el grupo popular

sobre qué opino yo de la presentación de esta comisión de investigación y los verdaderos motivos que están detrás de esta propuesta

este parlamento pueda ir más allá de donde ha ido la autoridad de la competencia aunque su naturaleza sea distinta y desde luego no va a poder llegar allí donde sí puede hacerlo la fiscalía

para que todos nos podamos situar con claridad ante esta cuestión primero tenemos que centrar el origen de la misma

los comedores escolares se realizaba mediante un contrato que tenía dos partes diferenciadas la primera consistía en la selección de las empresas que podían prestar dichos servicios

en la adjudicación de los lotes ya determinados a dichas empresas mediante contratos derivados y que debían de realizarse durante cuatro años con las empresas previamente seleccionadas

se encuentra con una denuncia por prácticas colusorias de las empresas adjudicatarias de los servicios de comedor que fueron seleccionadas el año dos mil once ante esto el gobierno actúa mediante el órgano creado al efecto que es la autoridad vasca de la competencia

dicta una resolución que condena a las citadas empresas por prácticas colusorias

el gobierno vasco está estudiando si se ha producido un daño patrimonial para en su caso ejecutar las acciones legales que sean necesarias para resarcir a las arcas públicas de los años y perjuicios causados lazarobaster jauna zuk esan duzu merke ateratzen

asimismo ha modificado completamente el modo de contratación lo que ha supuesto un ahorro significativo pero visto el resultado no es totalmente satisfactorio continúa

para mejorar el modelo de gestión de los comedores incluyendo la posibilidad de que cada centro público pueda elegir la forma de gestionar su comedor

eta jaso genuen ere earen aldeko botoa lo que sucedió es que

e impusieron su criterio y no salió la transacción también hay que destacar

el recorrido puesto y es que los centros en vez de pedir la gestión propiamente autónoma lo que pedían era entrar en el sistema general

siguiendo aquel acuerdo que adoptamos entre los distintos grupos aunque no salió hasta poner en marcha el actual proyecto piloto finalmente el gobierno vasco ha remitido ya señor lazarobaster a la fiscalía

a fin de que valore si se pueden derivar responsabilidades penales a este respecto hay quién dé más me imagino que aquí nadie nos volverá a decir como nos dijeron en su momento que estábamos defendiendo a las empresas porque claro

que me defiendan otros probablemente será por lo que ustedes no votaron la vez anterior estas medidas

este este es el enganche que utilizan los proponentes de la proposición para deslizar las sospechas de corrupción política con la que justifican su petición que me niego a denominar comisión de investigación por lo que luego explicaré esta primera fase o primer contrato del contrato marco

consistía en la selección de las empresas contratadas es aquí

centrando su argumentación en la actividad de los laboratorios araba

y en el funcionario representante del departamento de educación obviando por cierto decir que en el año dos mil diez dicho funcionario sustituye al de los años

último año en el que se realizó la contratación que hoy se pone bajo sospecha de corrupción cuando el actual gobierno comienza su andadura

ante el órgano administrativo de recursos contractuales que rechazó sus pretensiones y posteriormente ante el tribunal superior dejusticia del país vasco sala de lo contencioso administrativo número quinientos ochenta y dos barra dos mil doce

las pretensiones de los demandantes y en la que responde a cada una de las pretensiones incluyendo todo lo relacionado con el funcionario que se pone bajo sospecha

el nexo que se pretende con la posible corrupción del gobierno en esta sentencia queda meridianamente claro que no hayninguna actuación ilícita ni siquiera merecedora de reproche a la administración ni a esta

porque claramente lo dicen así los propios tribunales esto mismo se repite

de la autoridad vasca de la competencia por lo tanto señores en ningún momento en ningún momento desde el inicio ha tenido el gobierno según lo dicen los propios tribunales y la autoridad vasca de la competencia ninguna sospecha sospecha siquiera para de corrupción como pueden ver

la absoluta limpieza de la actuación de los gobiernos y la otra no menos importante por lo que diré a continuación

ponen el énfasis y donde ponen la posible trama y es que la fecha en que se realizó el contrato que es

porque los contratos posteriores sobre los que también se pronuncia la autoridad vasca de la competencia son contratos derivados de este y no hay nueva selección de empresas no hay nueva selección de empresas son las empresas ya contratadas y en base a los pliegos de condiciones determinados de acuerdo sin embargo

oyarzabal los proponentes ponen su mayor esfuerzo en implicar al actual gobierno

parece que no les importa demasiado cuando es materialmente imposible porque comenzó su mandato más de un año después de dicho procedimiento de selección el gran argumento que utilizó el señor oyarzabal en el pleno anterior celebrado sobre la cuestión en esta cámara

gobernaba el partido socialista con la colaboración del partido popular pero mandaba el pnv al parecer el pnv les escribió los pliegos y ambos lo aceptaron

y produciría risa además de vergüenza si no fuese porque ha recibido por lo que veo hoy el eco de algún otro grupo de eh bildu en este caso para plantear por motivos puramente electoralistas una comisión de investigación

como pueden ver hoy aquí los proponentes no están solicitando una comisión de investigación lo que piden es que se les dé una plataforma para extender su propia porquería y ensuciar la política vasca poniéndola al mismo nivel de corrupción que la española de ahí la comparación con los ere de andalucía

todo esto no tiene recorrido si no se ensucia al actual gobierno aunque como he demostrado con todo lo explicado y aunque solo fuese por las fechas de los hechos es imposible que esté implicado

ante el debate de una comisión de investigación si comisión de investigación sí o no sino ante un intento de ensuciar la política vasca por parte de quienes están tapados de porquería

su propia porquería a toda la política vasca hoy el señor oyarzabal ha tenido una intervención otra vez mentirosa y mendaz cuando habla de la nueva contratación

cuando se inicia el procedimiento ninguna de las empresas que han participado tenía sanción alguna sobre sí ninguna empieza el procedimiento empieza antes y además la autoridad vasca de la competencia no se ha pronunciado

este último contrato que usted ha intentado poner aquí

para nada ustedes estaban hablando de la corrupción y pedían la comisión de investigación estaban pidiendo

anteriormente y en este caso usted con una lectura absolutamente falsa y tendenciosa falsa y tendenciosa porque no estaban condenadas estas empresas está intentando implicar con esto algo que no tiene nada que ver con lo anterior

ni de nadie más que de ustedes en fin para terminar esta primera intervención

babestea eskari hori hori esanda ostean quiero terminar señor oyarzabal señor maneiro haciéndoles una pregunta

sino de la propia administración no implica per se la existencia de corrupción política

y sin embargo tratan de implicar este gobierno en un asunto de práctica colusoria no de la administración sino de unas empresas cuando las propias fechas de los hechos impiden tal implicación los actos colusorios de la propia administración no despiertan en ustedes ninguna duda de corrupción

pero con un argumento mejor que el de que fue el pnv
el que impuso al gobierno del psoe apoyado por el pp las condiciones contractuales eskerrik asko eskerrik asko arieta araunabeña jauna erantzunen txandara pasatuz mistoa upyd

constitución o no de una comisión de investigación señor arieta por si todavía no se ha enterado eso es lo que estamos promoviendo y lo que estamos defendiendo y lo que finalmente

en relación a esta cuestión no se trata en todo caso de una comisión de investigación que pudiera analizar la posible porquería que

en general lo que ha ocurrido en los últimos años en relación a esta cuestión no se centre tanto usted en este gobierno ni en el partido nacionalista vasco porque al fin y al cabo aquí lo que somos somos servidores públicos somos

por lo tanto el propósito nuestro debería ser defender los intereses generales de la ciudadanía vasca cosa que usted nunca hace en ninguna de sus intervenciones señor arieta yo no he hablado en ningún momento de corrupción no he hablado en ningún momento de trama no he hablado en ningún momento de bárcenas ni de pujol todo eso lo ha dicho

una comisión de investigación para detectar las posibles responsabilidades políticas que hubiera haber usted sí que ha insistido en la palabra trama y en la palabra corrupción quizás porque usted sabe más que nosotros pero en todo caso nosotros queremos saber

las razones por las cuales el grupo socialista y el grupo nacionalistas vascos van a votar en contra de la creación de esta comisión de investigación en contra de que se investigue lo que ha ocurrido se dice que ya se aprobó

sí pero en esa transaccional no se planteaba en ningún caso la creación de una comisión de investigación hay quien dice ya hemos llevado este asunto a la fiscalía

y sí haberlas políticas y por lo tanto estamos hablando de responsabilidades políticas

no estamos defendiendo a las empresas por eso hemos llevado el asunto a la fiscalía es que quizás ustedes lo que están defendiendo es a determinados responsables políticos o a determinados partidos políticos y es por eso que ustedes no quieren crear una comisión de investigación

se dice también como argumento para votar en contra de investigar no se ha localizado trato de favor dice la autoridad vasca de la competencia ya pero esto lo dice la autoridad vasca de la competencia y nosotros pensamos que tiene que ser este parlamento quien analice todo ello

subordinada a la autoridad vasca de la competencia es una cámara que tiene autonomía plena para proponer algo como esto y efectivamente llevar a cabo los trabajos que se propone por lo tanto la autoridad vasca de la competencia dice que no

trato de favor no que no haya trato de favor pero en todo caso ya digo que es este parlamento quien debe determinar si ha habido o no trato de favor y si ha habido o no responsabilidades políticas se dice también que no hay tiempo no hay tiempo suficiente para que desarrolle los trabajos esa comisión de investigación

entre todas las demás señor pastor el propio gobierno está aprobando proyectos de ley aun a sabiendas de que no hay tiempo material para que esos proyectos de ley se conviertan en ley y también se dice que se ha modificado el sistema de contratación que por otro lado es un sistema

no cambia nada es decir ni una sola de estas razones justifica el voto contrario a que se investigue qué es lo que ha ocurrido en relación a esta cuestión durante todos estos años no hay ninguna razón y usted insiste en que este gobierno

aunque así fuera quizás los anteriores sí vamos a analizarlo todo claro es que usted dice que no usted dice que no hay responsables políticos usted ya lo determina

algún responsable habrá estamos hablando de un quebranto económico de doscientos millónes de euros estamos hablando de una multa impuesta por la autoridad vasca de la competencia de dieciocho millónes de euros estamos hablando de una resolución clara de la autoridad vasca de la competencia que denuncia que aquí se ha producido un cártel

determinadas empresas para llenarse sus bolsillos algún responsable habrá señor arieta pero en todo caso nuestros argumentos son algún responsable político habrá los argumentos del grupo socialista y del grupo nacionalistas vascos es no hay ningún responsable político bien vamos a crear la comisión de investigación y así salimos de dudas qué miedo tienen ustedes

qué miedo tienen algún responsable político habrá efectivamente quizás usted conoce quienes son esos responsables políticos pero en todo caso vayamos a investigar verdaderas intenciones por parte de upyd señor pastor aclarar lo que aquí ha sucedido no tenemos ninguna otra intención y el señor arieta en ese típico lenguaje barrio bajero que le caracteriza habla de que nuestra intención es

y extender su porquería esto es una vergüenza que usted vuelva a plantear una cosa parecida al menos en nuestro caso queremos saber si efectivamente hay porquería detrás de esta historia tenemos dudas de que efectivamente hay porquería detrás del partido nacionalista vasco

tenemos dudas o teníamos dudas teníamos dudas teníamos dudas ahora las tenemos menos porque ustedes van a votar en contra de la creación de la comisión de investigación para tapar sus posibles porquerías

votarían a favor y además en este caso como en tantos otros parecidos cuentan con el apoyo socialista que en estos casos o casos parecidos siempre en el último momento y en el último segundo sale en defensa
del partido nacionalista vasco eskerrik asko maneiro jauna la casta vasca

otra vez salen ustedes a defender al partido nacionalista vasco otra vez vuelven ustedes a dar la posibilidad de que toda la posible porquería que existe detrás
del partido nacionalista vasco queda tapada eskerrik asko

vasca llamada partido nacionalista vasco eskerrik asko maneiro jauna

yo llevo mucho tiempo tratando de dar luz sobre este asunto

señor arieta cada vez que baja aquí pues trata de mezclarlo con otros asuntos y con otros casos de fuera de aquí

al gobierno sobre las cosas que suceden aquí yo soy parlamentario alavés oiga en álava también

señala a su partido hay buena parte de la dirección del pnv alavés imputada en el mayor caso de corrupción que hemos conocido

en relación a porquerías en lo que se refiere a álava señalan directamente a su partido y a mí me gustaría que se hablen de las cosas que pasan aquí

y de lo que tiene que ver con las responsabilidades políticas de nuestra comunidad no que nos dediquemos aquí a hablar

las cuestiones que les afectan como responsables políticos en nuestra comunidad

y si ustedes no tuviesen nada que ocultar permitirían

el partido socialista y el pnv lo que tratan es de tapar este caso de tapar este fraude de los comedores escolares por si acaso se ven salpicados y no quieren poner luz en este asunto

ni el pnv ni el partido socialista porque de lo que se trata es de efectivamente dilucidar

como su propio nombre indica se ocupa de discutir de defender la libre competencia entre empresas y defender la libre concurrencia en los contratos públicos la autoridad vasca de la competencia no ha entrado a investigar

porque no le compete simplemente ha venido a investigar si ha habido concertación

entre las empresas y ha demostrado que la ha habido y lo que nosotros queremos es saber si esa

en un caso concreto en un concurso concreto en un año concreto señorías como se trata de que

prolongada en el tiempo que afecta a concursos en años diferentes en legislaturas distintas y desde hace dieciocho años

para exigir una investigación porque cabe pensar

que hay elementos de juicios suficientes porque han sido siempre las mismas empresas señorías porque estamos hablando de un fraude multimillónario

a esas empresas les trae al pairo la multa que les ha puesto la autoridad vasca de la competencia lo que quieren es seguir ganando esos dinerales año tras año de la contrata mayor que tiene el departamento de educación

otros doscientos millónes más de sobreprecio en la contratación pues que dentro de diez años les ponga otros dieciocho millónes de euros la autoridad de la competencia

se permite ese fraude prolongado en el tiempo por qué cuando ustedes han decidido cambiar el procedimiento lo modifican para que todo siga igual y para que cuatro empresas se lleven todos los lotes de la contratación y también a precios máximos

para eso queremos la comisión de investigación para saber dónde estaba cada uno quienes han sido estos señores por qué la empresa que decidía pasar el filtro

de las empresas licitadoras resulta que era una empresa que no estaba inscrita en el registro de empresas certificadoras autorizadas para auditar sistemas de calidad eso es lo que queremos saber por qué por qué este funcionario que no sabemos si participó en un concurso en dos o en tres o en cuatro si con que participase en uno nos basta

no existe constancia de que tenga cualificación ninguna para llevar a cabo funciones relacionadas con la inspección o la homologación por qué se coloca un funcionario

para decidir sobre la homologación de la mayor contrata alimentaria

una comisión de investigación y si ustedes niegan a la comisión de investigación significa que ustedes no quieren depurar responsabilidades políticas ustedes no quieren depurar responsabilidades políticas ustedes quieren ocultar todo lo ocurrido no solo eso

a las contrataciones del gobierno vasco en los últimos tiempos lo que quieren es y eso es lo que nos duele y lo que nos lleva a pensar que hay algo algo más aquí es que lo que quieren es que sigan siendo las mismas empresas

no solo lo han querido así es que ustedes nos dicen oiga es que en el último contrato que atañe a este gobierno

a los contratos anteriores este contrato ni lo ha mirado la autoridad de la competencia hombre en cuanto lo vea y vea que son los mismos de siempre los que se llevan los mismos lotes

algo nos tiene que llevar a pensar que la autoridad de la competencia

va a decir lo mismo pero lo más importante es que ustedes si

no estaban señaladas todavía cuando se llevaron los contratos pero resulta que nos la han vuelto a jugar

pues lo que les hemos exigido y no han hecho es anulen esos contratos impugnen ese procedimiento

esos contratos a esas empresas y vuelvan a celebrar ese concurso pero ustedes se niegan a hacerlo ustedes quieren seguir beneficiando a las mismas empresas con contratos multimillónarios y eso es lo que tienen

no pueden entrar en la contradicción de oiga busquen responsabilidades en el psoe en eusko alkartasuna con nosotros no va esto será con los anteriores oiga si ha responsabilidades con los anteriores hay responsabilidades y eso es lo que tenemos
que dilucidar eskerrik asko oyarzabal jauna eskerrik asko termino ya señora presidenta me parece que hoy que el pnv y el partido socialista impidan

desde luego les inhabilita a ustedes para seguir hablando de transparencia

para hablar de transparencia solo faltaría no y al señor maneiro

ha usado aquí de la casta vasca no sé si significa que está pensando en pasarse a podemos o ha sido simplemente un exabrupto verbal porque les comprar el discurso

ni mucho menos que el parlamento tenga que quedarse de brazos cruzados

no ningún otro este parlamento el que ha instado a la fiscalía y el que ha exigido al gobierno que remita el expediente a la fiscalía y nosotros ya sé que la autoridad vasca de la competencia entiende solo de casos de competencia también es verdad que dice que no ha apreciado

a la fiscalía no le décimos que intervenga para hablar si ha habido o no libre competencia eso ya dice

le pedimos que investigue sobre todo el expediente que se le va a remitir por parte del gobierno vasco

que no ha habido actuaciones punibles lo habrá determinado y si determinada que las hay este parlamento tendrá la oportunidad

porque ha sido este parlamento el que ha instado al gobierno a que ponga ese expediente en manos de la fiscalía para que se depuren responsabilidades por supuesto

si se ha establecido o no un daño patrimonial y este parlamento también este parlamento no ha sido

y además que se estudie la posibilidad de otros modelos de gestión sabe cuál es el problema que cuando este parlamento el tres de marzo adoptó esa resolución usted se quedó absolutamente incomodo

sorprendentemente no lo respaldó porque entendió que se quedaba usted solo ante esa

y además como usted se dedicó durante los primeros compases de esta campaña mediática que ha querido montar usted por el tema de los comedores se dedicó a sembrar inquietud y dudas a los padres sobre que le estaban cobrando más de lo que se debía y que había una diferencia escandalosa entre el precio del servicio de comedores públicos y de la escuela privada y eso sabe usted que se deriva de las condiciones laborales y salariales

en los comedores de la escuela pública con el convenio de la administración general y lo que pagan en la privada

empeoren sus condiciones dígalo que cobren menos y que trabajen más que es lo que pasa en la privada como usted sabe

perfectamente en cualquier caso yo le reconozco que usted le sabe dar a las suposiciones apariencia de verdad le reconozco el mérito

que hasta empatizo con usted y comprendo lo que quiere hacer yo comprendo que ustedes necesiten como el agua en un desierto dar la impresión de que la corrupción política que es algo

este problema no les afecta solo a ustedes que les veo en encascada un día sí

porque necesitan poder extender la sospecha sobre todos para disminuir su culpa lo entiendo y entiendo que usted en lo personal y su partido necesiten montar algún tipo de campaña política que les saque del agujero donde ustedes solos se metieron yo eso lo entiendo pero una cosa es entenderlo y otra cosa es que usted me pida

y que colabore con su campaña de desprestigio y su campaña de extender la sensación de que oiga usted no es el pp el único que tiene problemas de corrupción política

de corrupción política y además usted ya da por hecho que aquí ha habido responsabilidades que ha habido connivencia que ha habido malas prácticas qué es lo que ha hecho este parlamento

a los poderes públicos a la fiscalía en este caso a que investigue todo lo que se derive de ese expediente que le remite el gobierno vasco nada más que eso a quien corresponde investigarlo y si de esa investigación se derivan otras responsabilidades

lo apoyaremos y además sabe usted perfectamente que esto es postureo porque a las fechas que estamos

hay muy poquito plazo si es que existe alguno para que pueda tener efectividad real esa comisión de investigación no sé si estos señores

pero en cualquier caso si no es en mayo será el mes próximo en el mes de junio dígame usted qué espera resolver en una comisión de investigación en quince días o en mes y medio como mucho más allá de aprovechar el viaje para sacar titulares en los medios de comunicación que le pongan a usted en una posición política un poquito más airosa

yo como no pertenezco al partido popular y creo que a cada cual le corresponde aguantar su vela

sin la colaboración de este parlamento eskerrik asko pastor jauna eh bildutik

hemen ustedes se opusieron a una comisión de investigación cuando les convino y cuando les conviene se oponen por lo tanto nada de tanta pureza cuidadito

nosotros miedo no tenemos ningún miedo lo que nosotros no queremos es mentir a la ciudadanía ni dejar por cálculos electoralistas

lo que están haciendo la posibilidad de dejar un halo de sospecha por ahí contra el pnv porque lo demás si no fuese así y ustedes fuesen consecuentes

la otra es una comisión de investigación solo se hace

usted sabe que no es el caso por lo tanto diga que no porque esto no es una comisión de investigación porque lo demás insisto ustedes tendrían que haber empezado a actuar hace tiempo contra gente de su propia bancada

si no lo hace es porque efectivamente usted sabe que no hay nada de eso pero tampoco utilice electoralmente esta cuestión no vaya de puro hombre y no se diga a los demás que tenemos miedo no nosotros lo que no queremos es mentir a la ciudadanía y si tenemos una convicción en un tema la defendemos

con respecto a usted señor maneiro usted que es el puro el limpio el defensor de la limpieza mire primero la fiscalía cuando analiza analiza la totalidad

para ver que efectivamente las empresas no han actuado desde el principio de confianza legítima por lo tanto no nos tome por tontos a todos haciéndose ustedes el tonto y lo mismo digo a los demás que han estado en ese tema al señor oyarzabal y al señor lazarobaster

sencillamente analizan saben lo que tienen que analizar lo que no va a analizar nada es aquí la supuesta comisión de investigación que quieren hacer si ya tienen ustedes escritas todas las conclusiones qué viene a contar aquí pero fíjese usted su incoherencia señor maneiro

usted el de la limpieza en el debate de presupuestos sabe lo que planteó

y por qué porque era un chiringuito del gobierno para emplear a sus afines eso dijo usted en el debate de presupuestos

las actas y dijo que hay que recentralizar la autoridad vasca del estado qué me está contando usted hombre mire

y como dice utilizando mi lenguaje barriobajero no miré sabe cuál es el lenguaje barriobajero el intentar hacer

que el de los demás es la de los demás es una actuación falsa

no usted ha venido de la mano de la mano del único grupo que tiene una sanción económica de la autoridad vasca de la competencia actuando desde la administración desde la diputación de álava y al frente su responsable su responsable que estaba al frente está sentado en esa bancada y usted no solamente no se ha aplicado

siendo la propia administración la actuante sino que ha ido de la mano a decir

han reconocido no tienen nada que ver con lo anterior y que están intentando implicarlo

con el actual contrato por lo tanto señor maneiro déjelo déjelo porque

pero ustedes son la otra moneda la otra cara de la moneda de la corrupción

el engaño el ensuciar la política vasca usted ya lo dijo usted se quiere cargar

cómo lo va a hacer y el partido popular como he dicho antes tiene que extender a todo el mundo la porquería nos decía el señor oyarzabal a ver imputados imputados oiga

de los suyos sus máximos dirigentes o sea que fíjese usted dice

cómo que se lo han vuelto a jugar no si no tienen una sanción tienen su derecho a presentarse nadie se lo puede impedir o qué pasa que no tienen ellos los derechos para reclamar y reclaman en los juzgados y demás

que para hacer una recisión de contrato tiene las causas están perfectamente tasadas y que si no se da el tipo correspondiente eso no se puede hacer tal vez si hubiese algún juego por parte de la fiscalía cosa que usted no quiere pues no sé si podría dar o no mire

indudablemente indudablemente pues porque no les a ustedes lo único que necesitan es poner a todo el mundo del mismo color es decir sucios para es que es la única forma que se sienten cómodos pero claro eso no sale eso no les sale sino pueden de alguna manera ensuciar al actual gobierno claro cuela muy mal

si luego resulta que el gobierno pues está absolutamente limpio bien no sé para qué vamos a seguir creo que las posturas están perfectamente claras pero insisto

nada de una comisión de investigación aquí nosotros vamos a decir que no a la atalaya que ustedes nos piden tener desde un punto de vista absolutamente electoralista y en el que su objetivo es poner a todos del mismo color muy oscuro sucio para poder ustedes tener alguna opción pero la ciudadanía vasca de tonta no tiene ni un pelo y seguro seguro sabrá poner

aukeretako bat da nos encontramos ante un nuevo capítulo de la historia de un expolio del expolio sistematizado y lamentablemente largamente consentido que trae como consecuencia que la unión europea por ejemplo

dos billones de euros al año a causa de la elusión y el fraude fiscal

millónes de dólares como consecuencia de la evasión de impuestos por parte

múltiples herramientas que estos les brindan algunas grandes empresas jefes de estado directivos de multinacionales

artistas en definitiva miembros de las élites sociales

y por ende de hacer la aportación que les corresponde a las arcas públicas para el sostenimiento de los servicios públicos

y todas disfrutamos son estas mismas élites las que se han beneficiado del rescate a la banca de la amnistía fiscal de las reducciones de impuestos injustificadas mientras las clases trabajadoras soportan los recortes sociales y tienen que escuchar que son sacrificios necesarios por haber estado viviendo

ante esta situación aquí no podemos quedarnos de brazos cruzados no debemos quedarnos esperando a que otros actúen por nosotros es muy fácil apelar a instancias europeas o escudarse en que este es un tema a nivel mundial y que por lo tanto las medidas deben de ser las planteadas por la propia unión europea

y así pensar que ya está todo hecho pero no no está todo hecho desde aquí se puede y se debe actuar sabemos que esta es una lucha titánica pero creemos firmemente que debemos tomar medidas a nuestro nivel sí obviamente pero medidas a fin de cuentas

propuesta hoy nos tenemos que alegrar del acuerdo alcanzado y queremos agradecer a los firmantes la voluntad

a alcanzar el acuerdo queremos agradecer especialmente al partido socialista

de hacer un acuerdo y de lograr un acuerdo lo más amplio posible proposamena oso argia izan da eta da ezagun dezagun behingoz hemen

una proposición no de ley que nosotros hemos acogido con interés sobre todo por dos razones

como ya empezamos a hacer en aquel veintiséis de septiembre del año dos mil trece con aquel pleno de fiscalidad el parlamento vasco como sede del conjunto de las instituciones y de la ciudadanía vasca

para hacer política fiscal política fiscal que luego tiene un desarrollo en las competencias de cada una de las instituciones pero

iguales ante la fiscalidad que busca que la progresividad de la fiscalidad se cumpla que busca que todos tributemos que se luche contra el fraude fiscal que se armonice que se evite la elusión fiscal

se avanzó muchísimo también en la lucha contra el fraude fiscal se creó una comisión de lucha contra el fraude fiscal y se abordó la interconexión de datos entre las administraciones

imprescindibles para poder luchar contra el fraude fiscal por lo tanto esta iniciativa de bildu que insiste en esa política

trata de reforzar una política fiscal que en su día tuvo muchas resistencias para que fuera abordada por este parlamento vasco

que para un país tan pequeño como el nuestro es muy necesario que haya una política común que haya una política de país y que luego esta se pueda legislar

la iniciativa que trae bildu digamos que está de rabiosa actualidad sobre todo por los papeles de panamá pero también por

muy frescas en suiza en andorra en luxemburgo es decir en determinados lugares ya no al otro lado del charco y en otros continentes sino

incluso en nuestra propia unión europea a la que pertenecemos y por lo tanto en este momento hablar de la lucha contra el fraude fiscal en un momento de enorme

por ese fraude fiscal y por esos paraísos fiscales pues yo creo que es importante los papeles de panamá que es lo más reciente si quitamos todo lo que está ocurriendo en relación con mario conde que también tiene que ver con la opacidad y con los paraísos fiscales los papeles de panamá yo creo que tienen dos elementos o ponen de relieve dos cosas que son

el primero que cada vez hay menos seguridad para los que hacen política fiscal opaca para los que hacen defraudación para los que

cada vez hay menos seguridad en cualquier parte del mundo cada vez uno está más expuesto a que los papeles aparezcan y a que uno se vea obligado a dar la cara sobre cómo está operando con sus recursos económicos en segundo lugar ponen también de manifiesto que

la obligación inmediata de actuar se forma un gran escándalo en torno a estas prácticas de corrupción económica y por lo tanto no hay prácticamente nadie que pueda permanecer indiferente y de hecho ya ha habido consecuencias políticas en muy pocas horas

los listados de los papeles de panamá y yo creo que estos elementos son elementos que ayudan y que contribuyen a que la lucha contra el fraude fiscal sea cada vez más fuerte más sostenida

sin cuartel haya una tolerancia cero con el fraude fiscal y que en función de nuestras competencias todos vayamos cerrando las puertas haciendo una legislación fiscal cada vez más segura menos interpretada por terceros que no dé pie a la elusión fiscal y que desde luego no permita

aquellos que están en el fraude fiscal y que están en los paraísos fiscales puedan tener una relación normalizada con la administración pública y que además cada vez la transparencia sobre todo esto sea mayor para que sea más difícil y más doloroso

transaccional que hemos firmado el grupo proponente con los tres grupos enmendantes o que hemos apoyado aunque uno de ellos no haya firmado por razones ya conocidas y viejas en esta cámara

es una transaccional que aborda este tipo de cosas que da un avance que le pone al parlamento

poniendo tareas al conjunto del entramado institucional que hay en el país vasco le da a la comisión de lucha contra el fraude fiscal dos encargos un encargo de poner en sus planes de trabajo la búsqueda de empresas vascas de sociedades de personas físicas

fiscales seguirles buscarlos y hacer que tributen donde tienen que tributar

con la normativa que existe haya una práctica un trabajo de información y de transparencia a la opinión pública a las instituciones de ese trabajo en esta comisión de lucha contra el fraude fiscal

la posición política que hemos adoptado comúnmente plantea que en la responsabilidad social de las empresas se incluya que no es posible una relación normalizada si hay empresas

por su propio pie o mediante filiales que estén operando en paraísos fiscales se plantea además dar una vuelta de tuerca a la elusión fiscal y efectivamente esto que sí está recogido también en aquel pleno de septiembre de dos mil trece

de un estudio a fondo tenemos que ver cómo se hace hoy la interpretación de nuestra legislación fiscal para evitar esa elusión fiscal

una línea delgada entre algo que no se puede considerar fraude desde el punto de vista de la legalidad pero que sin embargo es fraude desde el punto de vista de la legitimidad o desde el punto de vista de la ética por lo tanto también

y en esta propuesta conjunta se plantea también que haya una política fiscal europea efectivamente la lucha contra el fraude fiscal es una lucha federal es una lucha de

es una lucha intercontinental no es posible ir contra los paraísos fiscales desde espacios institucionales reducidos pequeños etcétera sino que hay que hacerlo de común acuerdo

lugares y con capacidades muy superiores por lo tanto hace falta primero una política fiscal europea porque con esa política fiscal europea

en igualdad los ciudadanos del conjunto de europa primero para tener políticas públicas y para tener servicios públicos pero en segundo lugar para luchar con más eficacia el fraude fiscal y contra los paraísos fiscales y por lo tanto hay un planteamiento de política europea que es absolutamente necesario yo quiero terminar esta intervención saludando el que hayamos dado este paso

a la ciudadanía es que nos ponemos de acuerdo todos no sé cual es todavía

pero que nos ponemos de acuerdo para que la lucha contra el fraude fiscal sea una actividad política sostenible sostenida sea una política de primer nivel y de primera preocupación

y yo creo que ese es un elemento a resaltar y a señalar como guía y también como ejemplo de lo que tenemos que hacer en el futuro que es seguir dando vueltas de tuerca hasta que el fraude fiscal se reduzca a lo mínimo en breve en unos pocos días o semanas sabremos

la actualización del fraude fiscal en euskadi este es un planteamiento que nos preocupamos de que se encargara y de que se pusiera a trabajar sabremos por tanto en qué cuantificación estamos

el fraude fiscal en el país vasco y yo espero que también en breve demos un paso más decidido en algo que venimos defendiendo desde hace mucho tiempo que la mayoría de los grupos se han resistido y es en cuantificar los

de la lucha contra el fraude fiscal lo mismo que hay una agencia tributaria en españa que se fija objetivos que los cuantifica

todo esto hay que hacerlo también en el país vasco hay que hacerlo dotando de más servicios y demás medios a la propia inspección buscando que haya más especialistas que probablemente tenemos carencia sobre todo en el plano de la informática que es la herramienta

es necesario reforzar ese segmento de la lucha contra el fraude fiscal tenemos que hablar de medios pero tendremos que hablar también de objetivos cuantificables hablando en términos de economía social probablemente en estos momentos no hay nada

para las instituciones y para las políticas públicas pero también para la convivencia y para la ética ciudadana que luchar contra el fraude fiscal contra los paraísos fiscales muchas gracias

únicamente para decir que votaré a favor de la transaccional puesto que los

y el texto firmado y puesto que las fuerzas también son limitadas únicamente digo que efectivamente

todos los grupos de la cámara gracias eskerrik asko maneiro jauna euzko abertzaleak

sabemos que no es fácil y que no todo se conseguirá solo cambiando leyes porque existen también otro tipo de circunstancias otro tipo de elementos

psicológicos y sobre ellos también es preciso trabajar baina gaur guk erakundeetatik

egin da arlo honetan eta gehiago egin behar da tenemos una normativa antiparaíso fiscal de gran rigor en el contexto internacional que además

para adoptar medidas de mejora cuando es necesario

que nuestras empresas pongan filiales en paraísos fiscales para erosionar bases imponibles aurrean daukat bizkaiko foru

a las estrictamente tributarias que son competencia exclusiva del estado en concreto se propuso adoptar medidas de carácter penal

de revisión de la figura del dolo eventual lo referente a los delitos fiscales de manera que se imposibilite su utilización como vía de escape para los defraudadores

y financiera cuyo objetivo sea la elusión fiscal se propusieron medidas en relación con el régimen de las sicav que se han comentado aquí o

estamos ante un

internacional que requiere que en nuestro caso en el caso vasco autoridades fiscales vascas tengan representación en los grupos de trabajo técnico a nivel europeo

y en la eliminación de paraísos fiscales por otro eta nazioarteko esparrua denez

y entre todos tenemos que trabajar para que se aborden la definición de qué es un paraíso fiscal una lista de paraísos fiscales y una

para luchar contra ellas a día de hoy siguen sin existir una definición

los define como países a los que fluye dinero desde el extranjero a los que se aplican facilidades legales y económicas

en su país de residencia y considera que son tres las características comunes el bajo o nulo nivel de impuestos la opacidad informativa con la que maniobran y la falta de transparencia en las operaciones además debería haber una lista única porque aunque se ha dado un paso

por primera vez en bruselas se daba una lista de treinta paraísos fiscales se debería hacer un esfuerzo por unificar esa lista porque por ejemplo en el caso de panamá que es lo que ha traído a la actualidad este tema panamá está en la lista de paraísos fiscales a nivel europeo y sin embargo en el dos mil once

ese tipo de cuestiones deberían evitarse y por otra parte se deberían seguir avanzando en la batería de medidas para luchar contra este problema contra esta lacra

pasos desde la comisión europea se tienen en marcha varias iniciativas que se empezaron a implementar y a adoptar

y se debatió en esta cámara también el martes

el borrador de la última propuesta en la que se obliga a las multinacionales a proporcionar información de país por país de sus beneficios y dónde deben pagar los impuestos se trata de empresas de más de setecientos cincuenta millónes de ingresos y

serían aproximadamente noventa por ciento de los beneficios a los que afectaría se han adoptado más medidas

el último informe el proyecto de informe sobre la propuesta directiva del consejo por el que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal

diciembre del dos mil quince con recomendaciones destinadas a la comisión sobre el aumento de la transparencia la coordinación y la convergencia en las políticas de tributación

enero del dos mil dieciséis con propuestas que tienen por objeto coordinar la respuesta de escala de la ue a la elusión sobre sociedades siguiendo los estándares mundiales elaborados

pero se siguen teniendo que dar pasos y dado que se me ha terminado el plazo

señor prieto nosotros vamos a votar a favor pero tengo que decirle que yo pensaba que la iniciativa era contra la elusión fiscal y se ha convertido en lucha contra el fraude y la evasión fiscal

transacción que ustedes han firmado con lo cual pues bien todos estamos de acuerdo pero yo pensaba que la iniciativa iba por otros derroteros que iba por tema de la elusión fiscal de las multinacionales de las grandes empresas que en fin

tienen residencias en distintos países y por ahí iba mi intervención en cualquier caso

seguiré hablando de eso que era el tema que nos traía

con la iniciativa con la que estábamos en parte de acuerdo porque claro no es lo mismo

ni evasión ni elusión no es lo mismo porque la elusión fiscal se hace por medios legales es legal ese es el problema de la elusión no es un fraude ni una evasión se hace por medios legales

pues aquí hay que ver qué es un paraíso fiscal porque esto de panamá queda muy bien pero claro se supone que un sitio es un paraíso fiscal

a ese país pues ahí están prácticamente exentos de pagar impuestos porque son rendimientos que obtienes

y claro en la unión europea pues la unión europea acaba de publicar una lista de treinta países que supuestamente son paraísos fiscales

que está confeccionada con países que coinciden en las listas de más de diez países de la unión europea la lista de españa es más amplia

un paraíso fiscal pero claro si nosotros miramos la unión europea y lo que pasa dentro de la unión europea pues poco más o menos tenemos que decir que en mayor o menor medida

son paraísos fiscales y voy a ver si me explico porque claro cuando francia sube los impuestos

pues hay una serie de franceses que se van a la city de londres por qué se van a la city de londres porque pagan menos impuestos

y no sé si hasta cogió la nacionalidad rusa que probablemente ahí se equivocaría porque con un paraíso fiscal suele ser un infierno para los residentes propios

rentas de fuera pero bueno no lo sé yo lo que le tengo que decir es que irlanda

está considerado un paraíso fiscal por muchos países en españa en los últimos ocho años se han invertido

incluido el país vasco de los cuales más de sesenta y seis mil vienen de dos países de dos básicamente holanda

pues porque holanda un inversor extranjero pone su sede en holanda los beneficios que obtiene en españa van a holanda y pagan cero

pues tendríamos que considerarlo paraíso fiscal a los efectos de elusión fiscal

lo mismo luxemburgo o lo mismo la city de londres o lo mismo bélgica o lo mismo austria

muy interesante verdad holanda nos denunció en bruselas a los astilleros españoles porque hacíamos dumping

y cuando estamos hablando de estas cosas pues son muy importantes ahora tenemos problemas con arcelor pero claro arcelor

cuando una empresa de una multinacional gana o pierde dinero pues también depende de los costes que esa multinacional

que luego se lleva a la sede oficial que tenga en cualquier país del mundo que a lo mejor verdad aquí sale negativo porque claro los costes que he cargado por los conceptos

en cada país de turno verdad ese dinero esos costes me los llevo son costes para la empresa aquí por lo tanto no tiene beneficios

y yo pensaba que estábamos intentando hablar de esto o que hablábamos de esto porque también

puestos a hablar de lo que es un paraíso fiscal pues un paraíso fiscal a efecto de elusión es cualquier sitio del mundo

y es evidente que yo creo que todos estamos de acuerdo en que estamos en contra de esto y que evidentemente

parto de esta base y de que todos buscamos soluciones para eso y yo creo que también estaremos todos de acuerdo

que es que mientras en la unión europea no haya una armonización no como ustedes dicen porque como lo han llevado al final al fraude y una política fiscal progresiva

un impuesto de sociedades armonizado en toda la unión europea y evidentemente cuando se tenga eso y los distintos países de la unión europea dejen de competir fiscalmente para atraer rentas de otros países

sí que se podrá además hacer presión en otros sitios fuera pero también quiero decirles que en fin el mayor paraíso fiscal del mundo mundial es estados unidos no sé si lo saben

que tiene tres estados en fin uno de ellos

dakota del sur que es el que se ha puesto de moda ahora y que en fin hay importantes multinacionales con sede

que también tienen filiales en estos sitios y todo esto es legal y todo esto es legal lo que hay que intentar es evitar

no se actúe en serio en esta materia pues vamos a andar todos muy mal porque es la única forma

en cómo se evita esto se pueda llegar a un acuerdo con estados unidos para evitarlo porque aquí hay mucho fariseo empezando por el señor obama

fraude fiscal y de muchas de estas cosas pero luego resulta que tiene allí

que no se las toque en ningún sitio yo por eso pues bueno votaremos a favor de la enmienda transaccional que han hecho

que falta la elusión fiscal que era a lo que veníamos a hablar y evidentemente parece que la unión europea en estos últimos meses en estos últimos meses

en este sentido parece que se va a exigir a las multinacionales que den publicidad de los ingresos que tienen en cada país no de los beneficios que declaren sino de los ingresos que obtienen

el ingreso por aquí y el gasto por aquí y como he dicho antes si cargo el gasto

si cargo el gasto que me lo llevo allí verdad por servicios prestados desde la sede social pues en fin

y yo sin más sí que espero que cuanto antes en la unión europea se pongan de acuerdo en armonizar el impuesto de sociedades en toda la unión europea y que se dejen de hacer prácticas

entre los propios países de la unión europea eskerrik asko damborenea jauna

azkenean proposamen hau tengo que agradecer a todos los grupos

pero sí quiero decir que lo he dicho en mi primera intervención en euskera ahora lo voy a decir en castellano que para nosotros esto no es una bonita declaración

nuestra propuesta inicial había cuestiones que considerábamos ineludibles

sino que realmente se tomaran acuerdos de acción acuerdos para que desde aquí se actuara contra los paraísos fiscales y señor damborenea

he hablado en todo momento de paraísos fiscales en todo momento en todo momento he hablado de la influencia que tiene la existencia de los paraísos fiscales

tributario y en otros aspectos por lo tanto

y ese es el enfoque vamos a hacer lo que podemos nosotros aquí siendo conocedores de que esto es una lucha a nivel mundial como se ha indicado por otros portavoces

se pueden tomar medidas se deben de tomar medidas y eso es lo que nosotros y nosotras queríamos hoy que se decidiera en este parlamento medidas concretas acciones concretas a tomar

que ha considerado oportuno desde eh bildu teníamos muy claro que había que plantear la actuación activa

para hacer un listado de las empresas que pueden actúan en paraísos fiscales de las empresas que están aquí y actúan en paraísos fiscales

y el punto número tres en relación a la responsabilidad social de las empresas

para que en un futuro la regulación que haya que hacer sobre la responsabilidad social de las empresas sea realmente eficaz y que aquellas empresas que actúen en paraísos fiscales se sepa y que por lo tanto no puedan estar haciendo grandes campañas de publicidad en las que limpien

mientras por la puerta de atrás llevan a sus clientes a paraísos fiscales y esa ha sido una de las cuestiones para que ese punto tres conste

los paraísos fiscales es cualquier país donde se pague menos bueno

que paraísos fiscales son aquellos que encima de que hacen que paguen menos impuestos

y la falta de transparencia de los datos bancarios la falta de transparencia de los datos tributarios son los que realmente caracterizan a los paraísos fiscales y lamentablemente

no podemos olvidarnos de todas las islas que

por el pacifico que muchas de ellas son grandes paraísos fiscales y ahí es donde tenemos el problema también pero bueno eso es otro cantar y ya se hablará por lo tanto para finalizar yo agradecer el acuerdo insisto en que vamos a hacer seguimiento para lo que aquí acordamos se lleve a buen puerto porque no se trata solo de acordar

guzti honen informazioa hemos recibido una buena noticia porque viene a demostrar que las trabas que nos encontramos muchas veces para tener una relación más directa y lógica con las instituciones europeas no nacen en bruselas sino en madrid se trata de la confirmación de que euskadi como haciendas autónomas que son tienen abiertas las puertas de par en par para participar en el programa europeo fiscalis eta bide horretatik

a la unión europea a que en el marco de los grupos de trabajo de código de conducta y fiscalidad directa del ecofin se continúe trabajando para evitar la erosión de las bases imponibles y el traslado ficticio interesando beneficios coordinando la respuesta a la elusión fiscal

debe realizarse con la participación directa de todas las haciendas europeas incluidas las que cumplen la jurisprudencia del tribunal

para ser consideradas sistemas autónomos eta hau oso garrantzitsua da

a efectos de elusión yo no estoy de acuerdo en que un paraíso fiscal lo sea porque sea haya opacidad porque es que lo son incluso sin opacidad claro y en este caso podemos hablar de panamá

de claro de doble imposición pero con gran bretaña con la city

el resto de europa no hay opacidad y yo por eso le decía en fin que la normativa primero tenía que ser en la unión europea y armonizar el impuesto de sociedades antes se ha sacado

yo solo sé que cuando se hace demagogia con estas cosas como se hizo aquí digo aquí en el país vasco

recaudamos cero porque se fueron todas y ese poco que pagaban aquí pues ahora lo pagan en otros sitios claro

eso cómo se compensa pues con los impuestos que se les suben a la clase de media de este país y de todos los países que son los únicos que pagan impuestos y eso ha ocurrido siempre y por eso

hay exceso pues resulta que la recaudación baja porque el que puede cambiar de sitio se cambia y eso es lo que hay que impedir que sean justos

y el problema de francia que se lo he puesto antes que queda muy bien o el de las sicav que tuvimos aquí que queda muy bien pero nuestra recaudación cero y los demás han crecido por qué porque se fueron de aquí y cotizan en otros sitios y esa falta de ingreso lo compensamos

al resto de los ciudadanos vascos en cualquier caso yo también me alegro de que todos nos hayamos puesto de acuerdo en que estamos en contra de la evasión y del fraude pero yo repito que mientras no se armonice el impuesto de sociedades dentro de la unión europea pues dentro de la propia unión europea

y es legal y como es legal pues las empresas seguirán haciéndolo porque es evidente que si pueden pagar menos pues van a pagar menos

cambiar todo el marco jurídico de la unión europea y a lo mejor lo que hay que hacer es empezar a forzar algunos países de la unión europea que se nieguen a hacerlo a forzarles

porque lo que no se puede es funcionar así haciendo trampa fiscal

nos denuncie verdad porque es que los astilleros españoles hacían competencia desleal fiscal